lehendakari jauna egun on guztioi hoy se debate una moción de nuestro grupo elkarrekin podemos para acordar una agenda fiscal vasca

y hoy visto el pacto del partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi con el partido popular creemos que esto es una necesidad y es una necesidad urgente pero lo más triste es que frente a esta necesidad ineludible para cualquier persona de izquierdas

escucharemos excusas para no querer entrar al debate hoy escucharemos al partido socialista de euskadi

partidos que deberían haber traído este debate a esta cámara partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi van a intentar rehuirlo porque saben que no hay forma decente de defender el pacto de despacho al que han llegado con el partido popular hoy quienes como el partido socialista decían en su programa electoral

una reforma fiscal sin que se pronuncie este parlamento van a intentar rehuir el debate porque el resultado del pacto fiscal con el partido popular es vergonzante

como en el fondo y sin embargo este debate sí es pertinente no es aceptable plantear ningún tipo de maniobra dilatoria

esta misma semana se ha estado a punto de registrar los cambios normativos en las juntas generales de álava

aquí en este cámara es pertinente hoy y ante las prisas y

y del partido popular estos contenidos son adecuados hoy

dentro de unos meses cuando ya no sea noticia lo dicen simplemente porque quieren que la famosa foto de la firma del pacto no siga fresca en la memoria de la ciudadanía vasca porque hoy si algo va a ser este debate es el día de la memoria la memoria

y de qué han dicho otros en este parlamento el día de ver lo que hoy les interesa callar hoy es el día de empezar a poner sobre blanco las flagrantes y sangrantes incoherencia de unos y otros y eso también tiene un nombre

el cinismo del todo vale el cinismo del donde dije digo digo diego hay un refrán muy castellano que dice

bocas de miel y manos de hiel nuestra propuesta

es muy sencilla tiene tres ideas principales la primera que este parlamento es competente para hablar de fiscalidad lo es conforme al estatuto de gernika artículo cuarenta y uno punto dos lo es

lo es conforme al artículo catorce punto tres de la ley de territorios históricos la segunda que hoy en euskadi hay una política fiscal

y las fuerzas progresistas no podemos quedarnos callado ante ella hay que darle la vuelta

es que esas fuerzas progresistas somos mayoría y por lo tanto solo hace falta voluntad política para acordarla en qué se concreta nuestra propuesta

converger con europa converger en presión fiscal con la media de los veintiocho países de la unión europea y eso significa pedir que en euskadi se paguen impuestos como se pagan en la mayor parte de países de europa ni más ni menos dos

que quienes tienen más de cinco veces el patrimonio medio paguen más que los que viven de las rentas de alquilar pisos o de los intereses de su patrimonio paguen los mismos impuestos que cualquier trabajador o trabajadora con una nómina tres que las grandes empresas con beneficios también paguen impuestos

que paga cualquier gran empresa en europa ni más ni menos y eso señores del partido nacionalista vasco no supone perder competitividad alguna

cuatro luchar contra el fraude fiscal y hacerlo de verdad marcando objetivos concretos y cuantificables

tan de sentido común que firmaría cualquier ciudadano ciudadana de euskadi son las que proponemos y las que proponemos porque ahora mismo en euskadi no se cumplen

exactamente lo contrario pasa que pagan más impuestos

que una gran empresa por sus beneficios o que un rentista y esto no solo es radicalmente cierto sobre todo es radicalmente injusto miren voy a ser sincero del partido nacionalista vasco en esta materia

no espero que se sume a estas propuestas pero el partido socialista

señora mendia señora castelo les lanzo tres preguntas para ver

son sencillas son claras a ver si tienen el valor de contestarlas

cree el pse que la fiscalidad en euskadi es profundamente injusta para los trabajadores y las trabajadoras

dispuesto a llegar a un acuerdo con las fuerzas progresistas ante esta injusticia respóndame de verdad

respóndame sí o no si su respuesta es sí apoyen esta moción

hace un año que decían la verdad en su programa electoral demuestren a la ciudadanía que la palabra de un socialista tiene valor demuestren que están del lado de los de abajo

sean valientes y planten cara a la patronal a confebask a la derecha y al partido popular

irónicamente que nuestros sistemas fiscales son una maravilla porque el que tiene más paga más y el que tiene menos también paga más y en euskadi con los pactos del pnv y del pse con el partido popular vamos por un camino aun peor

paga casi todo y al que tiene más y apenas paga encima se les hacen rebajitas fiscales

en esta cámara dan los números dan para hacer una agenda fiscal muy diferente

el pp con ayuda del pnv y el pse en euskadi hoy es posible dotarnos de un sistema tributario suficiente equitativo eficiente

que sea capaz de incentivar la actividad económica y la creación de empleo de calidad que apoye la transición energética

y mujeres eso es posible y sobre todo es necesario es necesario porque la competitividad estructural de nuestras empresas señores del pnv

territorio hay estructuras económicas y sociales modernas y cohesionadas personas formadas y menos desigualdad y esto es para lo que sirve una buena política fiscal un sistema tributario que como decía antes

porque converger con europa no es una opción es una realidad que nos va a afectar más temprano que tarde de ahí la importancia de adaptarnos

y sin sobresaltos antes de que las exigencias de europa nos obliguen a hacer los debates deprisa y corriendo qué realidad más distinta la de los países más avanzados frente a los ajustes pactados entre el pnv el pse y el pp el propio gobierno vasco

en repetidas ocasiones que partimos de un modelo fiscal con bastante menos progresividad y menor impacto en la economía que los modelos que hay en europa

se hace aún más regresivo a nuestro modelo de política fiscal nos aleja más aún de europa es una dirección

que no es buena para euskadi ni para nuestra economía y que no es la que demanda la ciudadanía vasca permítame una pequeña comparación con la media de la unión europea mientras la presión fiscal en euskadi es el treinta y uno coma cuatro por ciento del pib

como lo oyen siete coma tres puntos porcentuales nos separan de la media europea

dos coma seis presión media en euskadi uno coma siete cero coma nueve puntos porcentuales menos cero coma nueve y de verdad aún quieren bajar más la presión fiscal a las empresas el partido nacionalista vasco presume de tener modelo propio pero no nos engañemos

el pnv ha entregado la política económica de euskadi al partido popular hoy el pnv en su afán de mantenerse en el poder a toda costa ha permitido que la política fiscal la política más importante que tiene un gobierno en sus manos la dicte

el partido más alejado de la voluntad de la ciudadanía vasca el pnv presume de tener modelo propio pero no cuela porque se está viendo como es un calco del partido popular miren el señor azpiazu se ha pasado todo este año diciendo que en euskadi la presión fiscal de las grandes empresas es menor a la del estado

el señor azpiazu se hace el sueco para escurrir el bulto del pedazo saco que se ha tragado con este pacto con el partido popular y ya podía hacerse el sueco sí

cuando el pse estaba en la oposición solía recurrir habitualmente a la opinión del señor ignacio zubiri y le citaba una y otra vez y hacía muy bien pues miren

le cito textualmente la mayoría de las empresas vascas

inferior al de españa el tipo efectivo que es el importante es mucho menor realmente las empresas vascas no tienen derecho a quejarse de impuestos altos en relación con el estado esto decía del impuesto de sociedades el mayor experto de euskadi en fiscalidad pues bien

pactar con la derecha con la patronal con el partido popular

y esto es simplemente inaceptable pero

en cien euros per cápita ahí es nada cien euros por cada contribuyente vasco ese es el regalo de navidad que el pnv y el pp

oparia y frente a esto hay una realidad que esto solo es posible porque el pse quiere

hoy quisiera la patronal pagaría los impuestos que debe pagar si el pse quisiera los rentistas no pagarían menos impuestos que los trabajadores y las trabajadoras vascas

hoy euskadi se parecería más a europa y menos

y hoy la pregunta es si de verdad el pse quiere eso si de verdad el pse va a dar más valor a sus acuerdos con la derecha

una reforma fiscal si el pse ahora que es gobierno

señora mendia señora castelo esta pregunta no se la hacen de elkarrekin podemos

y saben el otro día un matrimonio militantes socialistas de toda la vida

y me dijeron que les avergüenza que su partido este pactando con la derecha señora mendia señora castelo piensen si de verdad ese matrimonio de eibar

el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones y que ellos votaron si de verdad van a ser cómplices necesarios de esa rebaja a la patronal si de verdad un socialista va a mirar a otro lado frente a una fiscalidad

si es que no lo van a hacer voten a favor de esta moción no defrauden a sus votantes no defrauden a sus militantes no defrauden a la mayoría progresista de este país pactando con la derecha y la patronal mila esker

porque la política fiscal es una cuestión fundamental en la vida de los y las ciudadanas de nuestro país y aunque algunos se empeñen en hacer ver que la política fiscal es algo complicado es algo lejano es algo que la gente de a pie no va a entender la realidad es que es

lo conozca lo entienda incluso lo pueda replicar porque

egingo politika publikoak garatzeko behar dugun diruari y esto no es algo nuevo que diga eh bildu hoy aquí lo hemos dicho en diferentes ocasiones y cada vez que traemos el tema de la política fiscal lo décimos

es hacer una política fiscal que encima un día era de una manera y era lo mejor que se podía conseguir el impuesto de sociedades al veintiocho y a la hemeroteca me remito era el mejor acuerdo posible en palabras de diferentes miembros del pnv y del partido socialista

la mejor opción era bajarla a un veinticuatro por ciento bueno allá cada uno con sus coherencias y sus deudas

pero la realidad es que esa reforma fiscal va a seguir la senda de una contra reforma fiscal del dos mil trece que ya se demostró fallida por mucho que algunos quieran hacernos ver lo contrario una contra reforma fiscal

incumplió sus propias previsiones de recaudación en más de mil millónes de euros era tan buena era tan buena las previsiones de recaudación se cumplían o no como siempre en el irpf pero el impuesto de sociedades no llegaban

ni a cumplir el cuarenta por ciento de previsiones hori geneukan

eta beraz gizarte zibilak dauzkan proposamenak entzun behar ditugula ere porque nosotros lo que queremos es consensuar un debate público entre todos y todas para

a las necesidades de la ciudadanía vasca y no que esté al servicio de grandes empresas de aquellos que más tienen que es al final

que aplauden las medidas tomadas nosotros creemos que respetando las competencias de cada estamento respetando los límites de cada uno

este parlamento debe dar comienzo de una vez por todas a un debate inclusivo

los agentes políticos los agentes sociales para que este país no se pare

que parece que es esperar y esperar a verlas venir y eso es lo que queremos eta hori da gura duguna eta hori da gure proposamena

lo que no podemos estar haciendo son retales porque es lo que se ha hecho se han hecho cuatro cambios para contentar

sin ningún tipo de visión global porque no puede haber visión global cuando quince días antes era lo mejor quedarse en un impuesto de sociedades de equis y quince días después le damos la vuelta a todo y ya está eso no es visión global eso no es tener un rumbo eso no es tener una estrategia fiscal

no lo es eso es poner la política fiscal

porque además y yo creo que hoy también lo voy a decir porque si no la política fiscal yo que llevo ya

por activa y por pasiva que en este parlamento no tocaba que en este parlamento no se podía mezclar incluso no se podía hablar en las negociaciones presupuestarias de política fiscal

es competencia de otros hete aquí que este año no solo es qué se hable señor damborenea como usted bien sabe

el eje central de la negociación es decir la política fiscal se ha cambiado en este país única y exclusivamente

por tener un acuerdo presupuestario en otra institución y eso no es tener rumbo fiscal

y por lo tanto desde euskal herria bildu ponemos sobre la mesa hablemos

cada uno que diga lo que quiera sin ataduras de tengo que pactar con aquel tengo que pactar con el otro pongamos cada grupo político nuestras propuestas y escuchemos escuchemos como he dicho a los sindicatos al mundo académico que tiene mucho que aportar en esto y a partir de ahí hagamos política fiscal
pero no hagamos política fiscal al salto de la mata porque es lo que ustedes han hecho eskerrik asko pinedo

pero tampoco es la primera vez ni la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la quinta ni la décima ni la veinteava

a hablar de política fiscal en este parlamento en esta legislatura y en la anterior claro que se puede hablar lo estamos haciendo iniciativa suya

se van a poner escusas para no debatir nosotros nunca hemos puesto ninguna escusa para no debatir no tenemos ningún problema en debatir con nadie ahora este pleno sí es una escusa

este punto no es una escusa para debatir sobre la política fiscal este

para criticar el pacto fiscal al que hemos llegado no es para debatir la política fiscal es para criticar el pacto fiscal sí

usted señor bollain toda su intervención pero

en su intervención nos ha dicho también van a decir algunos que es mejor debatir esto dentro de unos meses oiga vamos a ver ustedes con bildu pidieron hace diez días

que va en febrero no hemos sido nosotros que no tenemos ningún problema en debatir esto en diciembre en febrero en marzo en mayo en junio y en julio porque debatir está muy bien y para que queden claras las diferencias entre unos grupos y otros

nos hemos hartado de debatir y lo que queremos es hacer cosas que solucionen y mejoren la calidad de vida de la gente que es algo

el mostrar sus diferencias que en hacer cosas nos dicen ustedes que es que

oiga hasta en la constitución del setenta y ocho está recogido nos plantean

es el que acaben de llegar a este parlamento por primera vez

no significa que en este país no haya habido impuestos y un sistema fiscal

desde hace más de treinta años y le voy a decir una cosa usted nos dice que el que menos paga paga casi todo

porque el sistema que tenemos es bastante progresivo el que gana poco paga cero en este país el que gana poco paga cero no paga casi todo paga cero

el que gana un poco más paga un poco y los que más ganan son los que más pagan ahora bien usted

estar de acuerdo conmigo en que no vamos a coincidir ni con ustedes ni con bildu nunca en que queda muy bien decir que el que más gana tiene que pagar más

de hacer huir a todos los que ganan más y luego resulta que no hay nadie de esos que ganan más que paguen y luego le pondré un ejemplo que tuvimos en este país no hace tanto tiempo

luego me habla de la igualdad entre hombres y mujeres en el tema fiscal y yo desconocía

pagan más las mujeres o los hombres que los hombres y las mujeres

es que lo desconozco pero cuando ya el tema de la igualdad se lleva al extremo de plantearlo en todas partes si usted es capaz de decirme en qué impuesto hay esa desigualdad

a corregirlo y yo con perdón de los expertos fiscales y de los expertos aquí hay mucho experto suelto por ahí claro usted nos dice que no sé qué experto ha dicho

pagaban menos que en el resto de españa y entonces los empresarios vascos como son idiotas dicen queremos que nos apliquen la normativa de españa pues si este es el experto que ustedes tienen me parece muy bien nosotros no lo usaremos de experto nunca vale

el mejor acuerdo posible era el que había todos los acuerdos son mejorables y este acuerdo inicial

manifiestamente mejorable y yo creo que ha quedado sustancialmente mejorado la propuesta inicial y tenemos planteamientos muy diferentes claro que tenemos planteamientos muy diferentes y se lo he explicado al señor bollain ustedes qué plantean

ustedes hacen la demagogia barata de decir las grandes fortunas tienen que pagar más sí sí

las grandes empresas tienen que pagar más como si no pagarán más pagan más en el caso de las empresas el que más gana paga más sea grande pequeña o mediana

se paga en función del beneficio en función del beneficio y señor bollain

de las empresas y nos lo equipara a que ha habido una bajada del impuesto de sociedad cuando no se ha tocado el impuesto de sociedades en los últimos años y claro baja la presión fiscal la presión fiscal se mide sobre el pib

miles de empresas han cerrado han perdido dinero casi todas

por lo tanto se han bajado los impuestos un poco más de coherencia

que a veces baja la presión fiscal porque se ha caído la recaudación porque se han caído las empresas y el empleo

que es lo que se hizo hace tres años en este país a ver si nos enteramos un poco se subieron los impuestos en este país hace tres años sí señor bollain sí se subieron ya sé que ustedes no estaban pero así y todo se subieron y le voy a poner el ejemplo

hubo un diputado general del partido nacionalista vasco que le entró la vena social demócrata esta que de vez en cuando les entran a algunos

vamos a hacer que paguen más vamos a subir al veinte por ciento

y cuánto recaudamos cero sí cero se fueron todas

cero y qué ocurrió anda se nos cae la recaudación fiscal hay que subir los impuestos el irpf sí a esos a los que ustedes dicen que no o tal al final siempre se nos suben los impuestos a los mismos verdad

vamos a cobrar mucho más de los más ricos pues resulta que de los más ricos cobramos

cero pero quedó muy bien aquel diputado general quedó

lo trasladaron enseguida a gipuzkoa álava y a todas partes

y usted nos dice hay que saber hacia dónde se quiere ir en política fiscal oiga nosotros lo tenemos muy claro la política fiscal tiene que servir para garantizar los ingresos suficiente para pagar el estado de bienestar social que nos hemos dado y que cada año

pero la política fiscal tiene que servir para crear empleo estable y de calidad y tiene que servir

dinero ellos de renta disponible no para quitársela a los ciudadanos y que luego venga la administración a repartirla nosotros eso lo tenemos muy claro

repartirlo de aquellas maneras y qué quieren que les diga yo

a la propuesta inicial creo no sé se ha quedado claro que vamos a votar en contra

se me había olvidado decirlo vamos a votar en contra de su propuesta inicial vamos a votar en contra de su transaccional y

en una comisión especial aquí todos los meses hablando de

nosotros les diré que como tenemos muy clara nuestra política fiscal nosotros procuraremos que las juntas generales se aprueben medidas ahora ya está el sociedades

se modifique también el irpf bajando bajando y beneficiando

que son las clases medias y que son los que al final pagan los impuestos eskerrik asko damborenea jauna

tranquila si total lo haces bien no hace falta que te pongas

pero me he bajado algunas cuestiones antes de empezar a hacer la intervención para que usted se dé cuenta del cinismo político de la incoherencia con la que trabajan le voy a decir esto ya sabe usted que es una moción que deriva de una interpelación no hace falta que se lo cuente verdad bueno pues le digo en la página setenta y cinco

le diría algo del partido socialista pero la verdad han sido irrelevantes en esta negociación así que no perdamos el tiempo con ellos pues le ha debido usted pasar algo desde ese pleno hasta hoy porque nos ha dedicado toda su intervención

semana y yo voy a empezar mi intervención manifestándole algo que los socialistas tenemos claro y que no sé si usted lo tiene y es que sabemos para qué queremos discutir de fiscalidad para encontrar las herramientas que de forma justa y eficaz garantice los servicios públicos ese es nuestro objetivo la extensión de derechos sociales y la potenciación de la actividad económica generadora de empleo de calidad

que tenemos para qué la quiere elkarrekin podemos que desde luego no va por estas líneas sino para hacer una discusión y usted lo ha hecho aquí y lo ha puesto de manifiesto que intente subrayar diferencias que existen en muchísima menor medida de lo que usted pretende amplificar hoy en esta tribuna pero hay algo

y eso que se lo he preguntado directamente a usted y es por qué

para fijar los criterios para una futura reforma fiscal acuden con otro papel al registro ustedes para presentar esta moción en la que ustedes ya fijan esos criterios y a pesar de que le di la oportunidad en varias ocasiones durante esta semana para que me lo explicara

no lo hizo y utilizaré sus propias palabras las que usó

y le decía aquello de piensa mal y acertarás pues ese mal pensamiento me lleva a creer que usted lo hace porque tiene que seguir encontrando escusas no son escusas las que encuentra el partido socialista sino usted

una legítima decisión por otra parte de que no quieren acordar los presupuestos aunque desde el gobierno y desde los partidos que lo sustentamos les dijimos que podíamos atender a sus razones y he de reconocerle y eso es cierto que tiene contenidos en su moción que nosotros compartimos porque nosotros compartimos

con tipos fiscales la verdad es que en euskadi hemos tenido históricamente una presión fiscal superior a la del resto de españa y nosotros compartimos lo mismo que ustedes

y me imagino que usted no es desconocedor aunque ya he visto que como tótem de lectura usted solamente tiene a una persona que por cierto

y hay muchos de que el tipo nominal de convergencia del impuesto de sociedades a nivel europeo es de un veintidós por ciento porque es esto no lo que ustedes nos están planteando convergir hacia ese tipo nominal

y no puedo creer que usted no lo sepa se llama impuesto sobre el patrimonio

es un cambio de nombre de cómo se llama el impuesto porque la verdad entonces está muy alejado de nosotros que lo que nos interesa es centrarnos en que quienes más pueden

y es cierto y yo creo que esto lo compartimos no solamente con ustedes sino con el resto de grupos de esta cámara

no para erradicarlo en un cincuenta por ciento que es lo que usted marca como objetivo sino que nosotros creemos que no tiene que haber ni un solo euro que se escape por el desagüe sin pagar lo que le corresponde y fíjese si lo queremos que ese informe que ha hecho ese tótem

ni en gobierno ni en oposición ya podían tomar ejemplo otros y en un acuerdo presupuestario en la anterior legislatura introdujimos una partida expresamente para que se hiciera ese informe

además de hablar sobre tipos deducciones desgravaciones y diferentes figuras impositivas pues conseguimos que se creara una comisión interinstitucional de lucha contra el fraude

y que desde su puesta en funcionamiento aplica un plan integral y único para todas los tres territorios históricos en la lucha contra el fraude acordando por ejemplo medidas para obtener más y mejor información de las cuentas de los contribuyentes vascos para evitar su ocultación eso que no explicaron hace bien poquito en comisión o para el control telemático

y no le quepa a usted ninguna duda de que en esa línea piensa seguir el partido socialista y sinceramente nos gustaría coincidir con este en este camino con ustedes y con el resto de los grupos

de la fiscalidad verde y compartimos también que la perspectiva de género se integre pero no solamente en la política fiscal sino en todas las políticas que se despliegan desde un entonces no me hable usted de maniobras dilatorias ni de cinismo político porque claro tendría usted que tener un poquito más de memoria y tendría que haberse revisado como en el mes de diciembre del dos mil dieciséis ante una proposición de eh bildu el grupo nacionalista y el grupo socialista presentamos

hacer un pleno monográfico sobre fiscalidad para acordar aquí los criterios relativos a una futura reforma fiscal en aquel momento no intervino usted

y además de otras cuestiones que dijo dice porque votaron en contra

ustedes deberían ser los más interesados y las más interesadas en que en esta cámara se tuviera un debate serio y de mayor calado que el que se puede dar en un pleno

que de febrero del dos mil diecisiete que es cuando se dijo esto por elkarrekin podemos al pleno del control pasado en el que su portavoz le dijo al señor lehendakari

como si fuese algo novedoso pues ya había sido propuesto en esta cámara en febrero y ustedes lo habían

no interesaba ese tema les interesa ahora en diciembre como les intereso el año pasado en diciembre hacer una propuesta fiscal para poder vestir y justificar por qué ustedes

en lo mismo en lo que estuvimos el año pasado y luego ustedes han presentado una propuesta que nada tiene que ver con los criterios de armonización europea que aquí nos presentan para alguna de las figuras entonces no sé dónde quedan sus propuestas

no sé con quién las han acordado porque este es el fondo del debate porque por mucho que ahora nos traigan esta moción y en dos meses tengamos aquí un pleno monográfico que lo vamos a tener ustedes siguen con el mismo

no quieren acordar no quieren mojarse tenían decidido que querían simular una negociación presupuestaria pero que no iban a pactar

y lo saben y se están armando de excusas para no hacerlo y en ese timo de escusas lo que ha hecho usted es salir aquí a la tribuna a acusar a los socialista pues bueno no sé de los males

esta es su real realmente es su excusa lo que no quisieron lo quieren ahora en diciembre cuando ustedes saben que ya no tienen margen de maniobra y ustedes han fijado cuánto tiempo tiene que ser

cuando se traiga ese asunto los socialistas votaremos y tendremos un pleno monográfico y debatiremos de fiscalidad llevan ustedes aquí

y en los dos cuando ya estaba en marcha el proyecto se han dirigido a los medios y no a esta cámara y lo han hecho las dos veces entonces la primera puedo pensar que es bueno por un tema de recién llegados que no saben muy bien cómo funciona el tema la segunda ya la verdad por muy bien que quiera pensar de ustedes no puede ser

ustedes se han dirigido a prensa para decir cómo se pueden obtener más ingresos y hacen unos cálculos mil no sé cuántos millónes o sea les salen a ustedes los millónes con una facilidad

cada deducción y cuando los demás lo hacemos cuando además les décimos que hemos llegado a un acuerdo y en ese acuerdo hay una serie de modificaciones pues ustedes dicen o desconocerlo y siguen tirando de brocha gorda porque no quieren entender el acuerdo fiscal que ha logrado fundamentalmente porque saben perfectamente que lo que dicen no es cierto

nos interesa lo que realmente se paga y se recauda porque lo que nos interesa señor bollain es la suficiencia de recursos y la garantía de los servicios públicos y eso

gritando o diciendo todas las barbaridades que se le ocurran no vamos a eludir el debate han pedido el pleno monográfico y lo haremos pero ya les recuerdo que perdió usted la oportunidad

sabe que este es un debate ficticio que es un debate cínico y que lo único que están consiguiendo con ello y se lo dije además personalmente y se lo repito ahora es tener la excusa para justificar el no

finalizo diciéndole lo siguiente y téngalo usted en cuenta en euskadi gracias al partido socialista todas sus instituciones van a tener presupuestos y recursos suficientes para garantizar los servicios públicos

la actividad económica porque los socialistas señor bollain lo vamos a hacer posible y no se olvide que esto que le digo lo que hace es consolidar un escenario de estabilidad

y esa estabilidad lo que favorece es el progreso económico y la cohesión social razones señor bollain por las que el partido socialista decidió hace un año entrar
a formar parte del gobierno vasco eskerrik asko castelo

del pnv no espero gran cosa de los progresistas sí

nik uste dut creo que es bueno

huir de estereotipos en todos los ámbitos de la vida y en política también y creo que es bueno también huir del panteón de los dioses de endiosar a personas porque efectivamente el mundo es muy amplio los distintos ámbitos profesionales son muy amplios y

y no creo que sea muy positivo estar continuamente endiosando y contribuyendo a ese panteón de los dioses

que hoy quienes tenían que haber traído aquí el debate rehuirán el debate hoy es el día de la memoria y ya se lo han recordado gogoratu

eh bildu podemos y pp bloquean la celebración de un pleno monográfico sobre fiscalidad aurten zuek blokeatu zenduen zuek

eso no es un rumbo eso no es una

propuesta en el parlamento rechazada por ustedes y por ustedes por ustedes y por ustedes sino se hubiera cumplido la hoja de ruta la estrategia

que nos vamos a lo que ustedes están continuamente poniéndonos encima de la mesa y no hay quien se aclare

hoja de ruta ni estrategia lehenengo otsailean

adostuko dugun dena entonces no entendemos nada no entendemos nada vamos a discutir hoy

en febrero vamos a hacer un pleno monográfico después inmediatamente seguido vamos a organizar una comisión de expertos

después vamos a volver hacer otro pleno monográfico para debatir las conclusiones de la comisión de expertos

en algún momento les diremos a las juntas que tengan en cuenta qué lo de hoy

lo del pleno que no sé yo cuando va a ser si en noviembre o en diciembre porque son las juntas generales de los territorios históricos quienes tendrán que hacer los cambios normativos pero no solo eso es que además podemos elkarrekin podemos siempre saca a colación el debate de ingresos el debate tributario justo coincidiendo con la presentación del proyecto presupuestos del gobierno vasco

no es la primera vez pero nosotros hemos ido a buscar su propuesta y yo señor bollain se le agradecería

vendrían eso quiere decir que tienen que tener acciones concretas que no las vemos ustedes dan la rueda de prensa dicen cuánto tiempo harían y hablan

y no sé cómo van a ser las conclusiones propuestas concretas porque digo yo que para eso

uno de los impuestos perfectamente definidos con tipos que suben que bajan deducciones limites bonificaciones cuotas tributarias todo eso

si uno de los problemas de la enmienda de totalidad para el presupuesto de dos mil dieciocho

cuándo quieren que todo esto entre en vigor en qué presupuesto porque van a estar dos mil dieciocho todo el día con la fiscalidad en la agenda aclárenoslo eskerrik asko

porque ustedes han inventado una reforma fiscal que no es una reforma fiscal sino un acuerdo presupuestario y han hecho

incluso las juntas generales han tenido que retrasarlo y por eso también por esa improvisación ha cambiado también nuestra hoja de ruta sin más ni nada más

al parlamento vasco porque queremos que sea esta cámara la que lidere y la que decida esta reforma ya sé que algunos levantan siempre la voz para decir que no que no se puede que este no es el órgano competente bueno pues ya está bien sí

y no hay sociedad justa sin una fiscalidad justa y la nuestra no lo es no es justa porque tenemos un sistema fiscal que está sustentado fundamentalmente por las nóminas y por los impuestos indirectos y eso es injusto es un sistema fiscal en el que las rentas del capital paga mucho menos que las rentas del trabajo

paga menos un veintidós por ciento y eso es injusto

que dicen que el impuesto de sociedades impide crecer la economía que resta competitividad a las empresas y que si reduce o se elimina las empresas y los empresarios crearán más empleo

porque el impuesto de sociedades es un impuesto sobre el beneficio empresarial sobre el beneficio y por lo tanto no aumenta en nada los costes de producción solo se paga si hay beneficios todo esto era lo que decía literalmente en esta misma tribuna el señor patxi lópez hace escasos cuatro años le conocen verdad

de lo que ha venido defendiendo el señor lópez también debe ser un demagogo un populista radical

qué ha cambiado para la señora mendia para el señor totorika o usted señora castelo para que se traguen sus palabras sobre que no iban a bajar jamás el tipo nominal del impuesto de sociedades qué ha cambiado su programa electoral decía literalmente página sesenta y dos que había que convergen con europa igualar el tratamiento fiscal de las rentas de capital con las del trabajo

por qué votan en contra de lo que dice literalmente literalmente su programa electoral

y como el señor lópez pues no es precisamente de mi agrado pero cuando alguien tiene razón

dura menos que la caducidad de un yogur y hoy hacen ustedes buena esa afirmación del señor arzalluz pero que nadie se equivoque

podrá traicionar una vez más otra vez más su palabra y su programa podrá defraudar a los vascos y a las vascas que les votaron pensando que votaron cambio

pero esas personas tienen que saber que hay esperanza que en euskadi somos mayoría los que queremos que somos mayoría los que no queremos pactos con el partido popular y el partido nacionalista vasco que somos mayoría los que queremos ver una fiscalidad justa que respete a los trabajadores y a las trabajadoras de este país

y todo eso es posible y es posible a pesar de la dirección del partido socialista de euskadi hay una militancia socialista digna y de izquierda lo que no es una dirección socialista

dirección socialista digna de esa militancia y de esos votantes mire señora castelo han tenido más de diez meses para cumplir lo que dijeron

y tener un debate monográfico como decía usted y la señora gorospe y en estos diez meses no han hecho nada

como convidados de piedra hay fotos señora castelo que valen más que mil palabras y si va a haber un pleno

no gracias a ustedes ni al señor damborenea y no votamos a favor de esa enmienda señora gorospe porque quedaba corta tergiversaba y vaciaba la pnl original si hoy hay alguna posibilidad
de isiltasuna mesedez rebaja fiscal a la patronal es gracias a nosotros y a nosotras porque se ha visto

prefiere la reforma fiscal del pp antes que su propio programa electoral y termino dirigiéndome a la señora gorospe hoy ustedes podrían incluso votar a favor

al primer punto de esa enmienda que presentaron ustedes en febrero pero tampoco quieren ustedes prefieren sus pactos con el partido popular

para que en euskadi se siga haciendo una política neoliberal lo mejor es que sea el pp el partido menos representativo de esta cámara el que menos apoyos tiene de la ciudadanía vasca el más antisocial el que menos interés tiene en luchar contra el fraude fiscal el que dicte la política fiscal de este país bravo señora gorospe bravo señores del partido nacionalista vasco ese es su soberanismo

entero y diga lo que quiera señora gorospe llámenos demagogos y populistas invoquen con la voz impostada de la estabilidad institucional para tratar de escurrir el bulto de su responsabilidad pero con su pactos con el partido popular lo único

es la injusticia social no tienen ningún argumento

y solo descalificaciones baratas eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

como se dice en castellano lo mismo vale para un roto que para un descosido suficiencia de recursos

nos gustaría tener más por lo tanto no hay suficiencia de recursos

qué es estabilidad política cada uno la define como quiere algunos le llaman estabilidad política a la calma chicha bueno pues cada uno sabrá lo que quiere pero centrándonos en el tema que nosotros creemos que es el más importante y que creíamos que era el que se iba a debatir hoy en relación a la política fiscal hablan de rumbos y estrategias gorospe andereak esaten dit

non dago runboa hor bai bai es que si no os dormís algunos

no puede haber un rumbo fijado cuando el consejero de economía de este gobierno dice

no tiene absolutamente nada que ver con lo dicho por el consejero de economía no hay rumbo cuando lo que era válido el día

estas cositas que han pactado ustedes han tardado no sé cuántos meses en llegar a un acuerdo con el partido socialista porque al parecer tenían ustedes ahí

incluso dentro de su propia casa por lo que veíamos en las diferentes intervenciones de los miembros de su partido la realidad es que un día ustedes decían que aquello era

miembros de su partido lo decían este es el mejor acuerdo fiscal y diez días después diez días después donde dije digo

por lo tanto no vamos a entrar en esas cuestiones eta berriz ere ekartzen didazu otsailean hemen esandakoa ez esandakoa eta prentsak esandakoa jakina zure prentsaren titularra klaro porque claro aquí cada uno tiene el titular que le gusta

defendíamos que había que hacer un debate público un debate que se escuchara un debate que la ciudadanía pudiera ver

un debate al fin de cuentas de puertas abiertas que escucháramos todos y todas lo que dicen los partidos políticos lo que dicen los sindicatos por ejemplo o lo que dice el mundo académico

en despachos cerrados donde ustedes tachan lo acordado quince días antes le echan un poco de tipex lo cambian y lo presentan como

eso es lo que ustedes prefieren y nosotros hemos puesto hoy encima de la mesa una vez más la opción de hacer a posteriori un debate abierto y eso lo pusimos en febrero

es que no sé si reírme o dejarlo para mañana bai bai bai qué plazos y ustedes qué plazos qué plazos

retirar la propuesta para volver a presentar otra propuesta

para volver a presentar una propuesta que han acordado con el partido popular ahora les están diciendo que probablemente entre una cosa y otra hasta marzo no van a poder quizás entrar al debate de todo eso

cómo le van a hablar ustedes a las empresas y les van a decir qué es realmente lo que se va a pactar al final claro como lo llevamos todo atado y bien atado como decía aquel no hay ningún problema verdad pero esa es la seriedad

sí o no y ustedes me hablan de plazos

hombre por favor aclárense realmente qué es lo que quieren y no estén haciendo apaños en el último momento deprisa y corriendo alrededor de una mesa sentados o de pie

pero le queda bien estaba pensando en qué campaña estaría usted si en la interna de podemos o igual en las catalanas pero bueno

me reconocerá que como le he dicho al principio este debate es la excusa no es para hablar de política fiscal es para criticar el pacto fiscal y segundo

sobra todo sobra hasta el pleno monográfico

esta es su propuesta lo que ustedes han firmado los dos grupos un debate monográfico sobre fiscalidad

se hará una comisión especial durante tres meses para analizar una vez concluida

otro pleno monográfico para acordar las conclusiones que tienen que ser las que ustedes ya nos dicen aquí que son

hoy claro de esas conclusiones que dentro del pleno monográfico y la comisión especial y otro pleno después no sé cuándo será

va a llegar con las conclusiones que ustedes ya nos dicen hoy cuales son

de acuerdo pero oiga a partir de febrero

va a ser bueno y esto de los expertos fiscales yo le voy a decir una cosa

nosotros sí tenemos una propuesta fiscal hace muchos años hace mucho tiempo nosotros sí tenemos nuestro partido sí la tiene es pública

nosotros no necesitamos reunirnos cada seis meses con expertos de ningún tipo ya nos reunimos hace mucho tiempo no se la necesidad de estar

yo como le he explicado antes la diferencia es que nosotros sí queremos modificar determinados

fiscales y oiga esto de que el impuesto de sociedades no afecta a las empresas que las empresas no vienen aquí o van allí en función del impuesto de sociedades porque las empresas pagan en función de los beneficios usted porque cree

el domicilio fiscal aquí no ha venido ninguna porque yo sí conozco alguna que quería venir aquí

es más lo que me extrañó es que tuvieran el domicilio fiscal en barcelona

y nos vamos a madrid y querían venir aquí porque tienen todas las oficinas aquí

por qué se cree usted que todas las empresas tecnológicas mundiales están en dublín no sé le pregunto sus expertos son capaces de explicarle porque todas van a dublín por qué las empresas extranjeras

que quieren invertir en españa crean una filial en holanda sus expertos fiscales se lo han explicado no sabe por qué es

y es evidente que la fiscalidad atrae o expulsa empresas

pero mejor que los expertos mejor que los expertos y le tengo que decir una cosa porque que le preocupaba mucho a la señora pinedo cuando entra en vigor

tendrá efectos uno de enero todas las empresas saben ya cuál va a ser y cómo va a ser ese

no habrá ningún problema y yo creo que además están más contentas de lo que estaban antes lo cual es bueno para las empresas

es la capacidad de influencia que tiene el partido socialista para establecer políticas progresistas mientras ustedes se quedan cómodamente sentados en sus escaños sabe cómo se llama eso sabe cómo se llama se llama tener complejos miedo falta de argumentos

usted ha salido hoy aquí a insultar y sabe usted porque insulta porque no tenía ningún argumento si usted hubiera tenido argumentos sólidos

con mayor tranquilidad como no los tenía se ha agarrado a todo lo que ha podido mencionando bueno no sé

que si vamos a tener aquí un pleno monográfico es por ustedes es que hay que ser cínico porque en febrero de dos mil diecisiete unieron sus votos ustedes

y sabe porque no lo quería porque en febrero a usted no le interesaba

porque sus compañeros cuando salen a intervenir de una forma más sosegada lo que vienen a decir es que se tranquilice confebask y el señor larrañaga porque lo que ahora mismo está lastrando la recaudación del impuesto sobre sociedades son los incentivos fiscales y las bonificaciones que están aplicando algunas empresas

transnacionales no consideramos necesaria una subida del impuesto de sociedades eso lo decía aquí en febrero para negar nuestro pleno monográfica el señor becerra

para el pacto presupuestario que lo hicieron el año pasado que lo están repitiendo ustedes ahora lo que no le puedo permitir es que usted aquí baje y como no tiene ningún argumento me falte al respeto a mí y a al partido socialista ni a su dirección porque mire usted el partido socialista tiene una dirección

la fiscalidad y para que quiere la estabilidad en las instituciones ustedes

y cuando la tienen la cambian y si no la quitan entonces

igual a ver lo que les dura porque llevan ustedes una temporada de cambios que como para andar hablando

y además se lo dijimos en el anterior pleno no vamos a entrar a las cuestiones que ustedes tengan internamente pero les encanta airear la de los demás

con el que usted dice que habló que por cierto es curioso que hablen con usted que le conocen en casa y justito y no hablen con el secretario general que está en eibar pues resulta que también estaba por allí ese día el día que habló con usted otro compañero nuestro de este parlamento que está justo detrás mío

porque no habían sido capaces de apoyar a un presidente socialista para no tener en este momento un presidente del partido popular aplicando recortes que por cierto

de algunas cuestiones relativas con los trabajadores con su situación y tal pero es allí donde se podía haber hecho el cambio pero

los recién llegados los puros y los castos a sentarse desde la comodidad

señor bollain lo que hay que tener es acuerdo y ustedes tienen miedo a acordar tienen miedo a significarse y sabe usted porqué tienen miedo porque les ha pasado no solamente aquí les ha pasado en cataluña y en el resto de españa porque ustedes tienen sus hojas de ruta

y el partido socialista no va en titulares de prensa y ustedes se han agarrado exclusivamente al tipo nominal porque no quieren hablar de lo que realmente es importante en el impuesto de sociedades que es el tema de las deducciones de las compensaciones y del resto de instrumentos y de elementos que configuran

y tampoco lo dicen otros grupos que hubo una portavoz económica de eh bildu por cierto a la que yo la tengo en bastante aprecio porque es una persona que cuando habla sabe de lo que habla que nos dijo en febrero de dos mil diecisiete cuando ustedes se negaban aquí

nos decía no estamos hablando de subir el tipo esto lo decían

en eso podríamos bajarlo podemos bajar el tipo si realmente lo que hacemos es que todo ese entramado de deducciones que tiene este impuesto de sociedades que hace que ese veintiocho por ciento en realidad

de eso podríamos hablar porque para nosotros en aquel momento eh bildu

pacientes somos y aquí les esperamos y veremos le recaudación del impuesto de sociedades porque usted y se lo dijo el lehendakari

y las deducciones y veremos la recaudación que es lo que le importa al partido socialista y no salimos aquí a insultar

argumentos y si usted quiere un acuerdo fiscal lo primero que tiene que saber es que tiene que haber acuerdo

los mismos los mismos despachos a los que van ustedes los mismos entran por la misma se sientan en las mismas sillas en torno a la misma mesa hablan con las mismas personas y vuelven a salir por la misma puerta los mismos cerrados no sé si le parece a usted que son cerrados tal vez

dagokion leku guztietan eta esan duzu hoy podría votar usted ustedes señora gorospe el primer punto

de nuestra enmienda porque es prácticamente igual al que nosotros le propusimos

ustedes han traído un pleno monográfico de fiscalidad que está aprobado que lo vamos a hacer ya está por qué andan repitiendo la cuestión es por qué votaron en contra entonces la cuestión es esa por qué votaron en contra ustedes nosotros ya tenemos claro que se va a celebrar el pleno monográfico de fiscalidad

aprobar pues algo así como el parlamento vasco insta al parlamento vasco y sobre todo a sus grupos parlamentarios a que respeten los acuerdos adoptados y no estén continuamente planteando reiterativamente los mismos debates eskerrik asko

una visión del muro que nos dio una mujer brillante y comprometida en este mismo parlamento helena maleno garzón ella nos pidió que estuviéramos alerta con la construcción del muro porque los muros nos dijo

nos hacen creer que quien viene de fuera es una amenaza porque los muros fomentan el racismo y la xenofobia porque los muros a la larga repercuten en nuestra convivencia

e inmigración clandestina por qué y por haber hecho llamadas de auxilio a los equipos de salvamento marítimo para avisarles de pateras

a la deriva o desaparecidas desde este parlamento que la invitó que la escuchó por su experiencia por su compromiso con las personas quiero enviar un abrazo sentido a esta mujer valiente leal a sus convicciones besarkada bero bat helena maleno

egun on hoy estamos aquí para debatir una iniciativa que tiene mucho que ver con la altura democrática de este gobierno y la altura moral de euskadi

como única medida a una situación grave de vulneración de los derechos humanos es ni más ni menos mirar a corto jarraitu egingo dira etortzen eta hiltzen

izan behar dugu porque hablamos de personas que salen de su país de origen tratando de alcanzar una vida mejor y ya sabemos que eso ha habido siempre y siempre

algunos tuvieron que ser también polizones aquí lo somos en la actualidad en tiempos de crisis aunque las y los jóvenes vascos que hoy salen al mundo han nacido en el lado adecuado y no tienen que poner en riesgo sus vidas y desde luego porque somos tierra de tránsito y destino

porque los movimientos migratorios son tan viejos como la humanidad sin embargo la militarización de las fronteras

la inexistencia de vías seguras para las personas y políticas cada vez más restrictivas en materia de derechos humanos las guerras las empresas transnacionales e incluso el cambio climático

y desde luego empeorando el tránsito en que las personas que quieren migrar pueden hacerlo y la construcción del muro en el puerto de bilbao así como los asentamientos que se dan en torno a él no son ajenos a esto como no son ajenas las personas en tránsito que hay en euskadi y que van en aumento mientras que las responsables institucionales

y esto no es tolerable y no es tolerable porque faltaríamos a nuestro mandato con una ciudadanía que nos ha dado ya sobradas lecciones de implicación y voluntad para con las personas migrantes y refugiadas pero sobre todo porque faltaríamos a nuestro deber como representantes públicas con respecto al complimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos

hoy sobre todo porque este tema se viene visibilizando por una serie de intereses meramente económicos tanto desde los medios como desde las instituciones y eso no puede ser no puede ser que se priorice el control sobre la protección a pesar de que esto parece que se torne habitual en los partidos del gobierno se ve que lo del control de las ayudas les ha cogido ahí el gustillo a criminalizar a quien peor lo pasa

de verdad creen que poner un muro es una solución para garantizar esta seguridad

tenemos claro que han servido para una cosa es cierto para vulnerar derechos para crear mafias para acumular muertos

de la mañana a la noche leíamos veíamos escuchábamos muro de la vergüenza muro de la infamia cortina de hierro por fin ese muro que merecía caer calló pero otros muros brotaron siguen brotando en el mundo aunque son mucho más grandes que el de berlín de ellos se habla poco o nada

casi nada se habla del muro de cisjordania que perpetua la ocupación israelí en tierras palestinas y será quince veces más largo que el muro de berlín

por qué será decía galeano que hay muros altisonantes y mudos muros señoras y señores ciudadanía nosotras nos negamos a hacer parte de un territorio en el que los muros sean mudos y es por ello que hoy vamos apoyar la proposición de eh bildu

también sabemos que aunque las problemáticas y las llegadas no son iguales ni obedecen a las mismas causas

no nos llevan a soluciones que apuesten por la convivencia y los derechos humanos tiene que haber otra salida tiene que haber otro modo

como respirar a través de una bolsa o de una botella para evitar la carga de ce o dos y que así no les pille la policía en cualquier momento tendremos una noticia de esa que estoy segura que ninguna queremos escuchar de esa de la que ustedes dirán que no somos responsables pero en cierta medida todas lo seremos también sabemos que estas personas no quieren ser visibles también sabemos que no se debería permitir que nadie se juegue la vida e incluso somos consciente de la dificultad que pudiera suponer hacer un enfoque enmarcado en la legalidad vigente que permita apoyar

soluciones para todas no solo para las mercancías y es que esto no se para con muros no se arregla con muros lo único que los muros hacen es generar división generar riesgo de impunidad tras ellos y riesgo para las vidas de quien solo intentan buscar para tener algo que de momento no es más que mera supervivencia por ello desde elkarrekin podemos creemos que es preciso buscar caminos hacia el respeto a los derechos humanos hacia la dignidad de las personas no muros que nos dividan e instalen en el imaginario colectivo la idea de un ellas contra nosotras o de un ellas

en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de los ríos ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y el agua no son libres en cambio

en inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible viajan desde el sur al norte y desde el sol naciente hasta el poniente porque les han robado su lugar en el mundo les estamos robando su lugar en el mundo hoy con esta proposición transaccionada con eh bildu décimos un no rotundo

de los derechos humanos porque este muro solo nos lleva a retroceder en el tiempo a retroceder como seres humanos y como administraciones garantes de derecho decía josé saramago somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá

y es que resulta cuanto menos inquietante la perspectiva de información que se difunde sobre la nueva infraestructura de transformación urbanística de bilbao un eufemismo para no hablar de lo que es un muro de la vergüenza nos tratan de convencer de que es un tema meramente económico un tema de recursos un tema de seguridad pero no podemos ni debemos poner los intereses comerciales

del ferry podemos y debemos sin embargo poner en el centro de los discursos las políticas y las medidas los derechos de quienes en su desesperada búsqueda de un futuro se ven obligadas por las actuales políticas migratorias a buscar alternativas que ponen en riesgo sus vidas hablamos

se habla de avalancha de invasión de problemas de higiene pública de campamentos ilegales de infraestructuras críticas de miedo a que no sean lo suficientemente seguras se habla de drama para la industria

no es una cuestión de refugiados sino de inmigración legal dando por sentado lo que dice sin decir que es que los que están en el puerto son

en un cargo público que nos representa en teoría a todas no tendría que escuchar semejante horror

o iraquí no son ilegales porque ninguna persona lo es estas personas son seres humanos y como mucho se encuentran en una situación administrativa irregular pero sobre todo estas personas son vecinas y vecinos temporal o permanentemente vecinas y vecinos

muy canalla denigrar doblemente a estas personas y sobre todo es peligroso desligarlas de su ser sujeto de derecho nosotras no vamos a colaborar con esto ni con el muro ni con la criminalización de los derechos de las defensoras de derechos y de las personas que se juegan la vida para ejercerlo euskadi es una tierra solidaria una tierra de acogida

que no quiere participar de puertos abiertos solo a las armas que matan niñas y niños en yemen

decía en su declaración institucional que las instituciones pedimos y ofrecemos un compromiso y lo decía

y legalidad construir este muro es garantía de aplicar estos principios me gustaría que me respondieran nosotras no estamos de acuerdo y para ser coherentes con nuestros discursos con nuestras declaraciones y sobre todo con la defensa de los derechos humanos nos toca

cómplices invitamos a que el resto de grupos con representación en esta cámara

no queremos entrar en lo competencial en la procedencia de aprobar o no esta propuesta porque esto va de estar o no estar firmes en la defensa de los derechos humanos y es

nos plantamos en la defensa de los derechos humanos y hacemos una apertura a situarnos políticamente en la protección en la justicia

y a vivir vidas que merezcan la pena ser vividas sin encontrarse con un muro
que se lo impida besterik ez mila esker eskerrik asko guanche

señora guanche me parece que su discurso es de lo más lamentable

porque hablar de derechos humanos en este caso

que se puede hacer en la frontera de méxico con estados unidos si quiere usted en la de melilla si quiere usted en el este de europa

de verdad me dice usted que somos una tierra de acogida y que es lamentable que les pongamos un muro para que se escapen pero somos de acogida

un poco de coherencia sobre todo cuando se habla tanto de derechos humanos y se maneja tanto los derechos humanos desde cuándo existe el derecho humano de asaltar la carga que se va a embarcar en un buque eso es un derecho humano

es un derecho humano de verdad la representante de eh bildu nos ha dicho que vamos a hablar de seguridad y que la seguridad y los derechos humanos no están reñidos y efectivamente no están reñidos

porque no sé por qué hablamos del puerto y no hablamos del aeropuerto o qué ocurre

cargas sí aviones no el puerto de bilbao está obligado legalmente en españa y en europa

y eso significa que tiene que haber un control de todo lo que entra y sale de ese puerto sean personas mercancías vehículos de todo eso es una obligación

y el problema la señora guanche nos decía que el problema es que el muro

señora guanche el puerto de bilbao como todos los puertos está cercado tiene cercas

se rompen las cercas se arreglan cuando se vuelven a romper

o hay que quitar las cercas quitamos también las del aeropuerto

de una compañía pues le voy a explicar brittany ferries aunque le pueda parecer lo contrario es una compañía francesa

en una línea prácticamente la única de pasajeros desde bilbao

pero básicamente básicamente el negocio es el traslado de mercancías tanto en el ferry como en el otro barco porque tiene dos barcos y

lo que pasa en estos casos estos albaneses que usted dice en fin que creo que ustedes lo saben

que han trabajado con ustedes se lo han explicado no son ilegales

tienen papeles oiga europa

y tienen visado de entrada en europa lo que pasa es que inglaterra gran bretaña no lo firmó

pero esto lo sabemos todos ustedes también ustedes también

con estos señores y en inglaterra no los quieren ni ver y sabe usted por qué no los quieren ni ver

porque saben a qué se dedican allí y saben que llegan aquí con dinero con móvil que los fines de semana como no hay barcos de bilbao a inglaterra y sí hay en santander pues cogen el taxi y se van a santander

y bildu también lo sabe y bildu también lo sabe y cuando se meten en la carga en un remolque

yo no sé si ustedes sabrán pero sí es un derecho humano hacer sus necesidades

a inglaterra y la recibe la empresa dice

que ya no vale entonces la empresa que ha exportado vía puerto de bilbao esa carga a inglaterra dice pues igual tengo que cambiar de puerto porque el puerto de bilbao no es seguro para mi mercancía ni para la carga

por qué porque por cada inmigrante que coge de estos que los cogen todos porque los están esperando revisan todos los contenedores y todos los remolques uno a uno los cogen todos y le ponen una multa a esa compañía francesa

acompañados de dos personas que luego hay que pagarles el viaje a inglaterra otra vez en el avión de vuelta y le cuesta siete mil euros a esa compañía francesa

le voy a decir cuál sería la fórmula de no hacer muro ni vallas

quitamos la línea dejamos de tener desde el puerto de bilbao una línea comercial con inglaterra y se acabó el problema

el levantar un muro es la solución pues probablemente no

quitar la línea esa sí es la solución

y a santander quitamos la línea del puerto de bilbao

y se acabó la historia y ya no tenemos problema y ya no se vulneran derechos humanos ahora

y aquellas empresas que quieran exportar mercancías a inglaterra pues tendrán que utilizar otro puerto

les saldrá mejor les saldrá peor pero este no es un tema de derechos humanos como nos han venido ustedes a contar aquí y lo saben este es un tema de perjuicios muy graves y de seguridad sí de seguridad de seguridad incluso para ello de seguridad incluso para ellos

porque vulnerar los derechos humanos de las personas es permitir que viajen de esa manera

eso sí es vulnerar los derechos humanos y ustedes nos están planteando que se permita hacer eso sí sí señora guanche ustedes nos dicen qué vergüenza no hay que poner ese muro vamos a dejarles que sigan viajando así

yo le digo mire la solución más fácil quitamos la línea bilbao inglaterra y ya no habría problema

si se les ha ofrecido quedarse y usted lo sabe y los servicios sociales del gobierno vasco lo han hecho y han renunciado

porque no quieren porque no tienen ese problema su problema es llegar cuanto antes a inglaterra y quieren llegar a inglaterra porque es evidente que allí tienen los negocios que tienen

porque le repito son los únicos que ganan dinero con ello eskerrik asko damborenea jauna

jaunari yo creo que este tema hay que tomárselo con muchísima sensibilidad con muchísima cautela y creo que intentar generalizar y

son delincuentes creo que no es lo más acertado es gente que es

de estas personas que llegan al puerto de bilbao creo que no es lo más precisamente creo que en esta cuestión se está centrando mucho el tema

allá de todo eso hay varias cuestiones principalmente dos cuestiones

ambas una cuestión perdón competencial otra cuestión humanitaria y una circunstancia son las circunstancias la problemática que subyace

el puerto es competencia del estado no del gobierno vasco lógicamente es el gobierno vasco el que nombra el director

hay empresas que se rigen por un derecho privado por el derecho internacional hay una serie de obligaciones que cumplir una serie de cuestiones que garantizar una ley que cumplir que nos puede gustar más o menos pero que en estos momentos es la que es vigente y evidentemente no podemos

desde nuestra posición podremos intentar que esa normativa que esa legislación cambie a mejor hay competencias en materia de seguridad que siempre también no suelen facilitar este tipo de cuestiones por qué porque en cuestiones de orden público y seguridad

porque en cuestión de extranjería tenemos a la policía nacional y porque en cuestión de puertos y aduanas tenemos a la guardia civil no es fácil de gestionar una cuestión como esta pero como decía creo que principalmente estamos hablando de unas circunstancias de una cuestión humanitaria más allá de lo que puede ser la gestión de lo que pueden ser las competencias o

cuestiones de seguridad cuestiones administrativas estamos hablando de personas migrantes que principalmente vienen de albania que no son migrantes que quieran establecerse en nuestro país en nuestra comunidad autónoma sino que están de paso aquí por qué porque su objetivo es llegar al reino unido eso también dificulta algunas cuestiones y no lo podemos obviar son personas que en determinadas circunstancias llegan aquí intentando coger el ferri intentando buscar esa salida hacia el reino unido y se encuentran aquí con determinadas

ellos están buscando su proyecto de vida ellos quieren buscar una salida mejor pero creo que el calificar a esas personas de refugiadas

son migrantes es cierto que les unen cuestiones que son muy similares

porque en algunos casos están huyendo de la guerra porque están huyendo de situaciones de violencia porque están huyendo de situaciones de pobreza porque buscan un futuro

porque pasan hambre porque pasan situaciones muy calamitosas y eso les une les une pero creo que tenemos que distinguirlo como decía son personas que están en euskadi de paso están de camino a buscar un futuro que está en el reino unido pero que evidentemente en su paso pues se asientan

vida en santurtzi son asentamientos que no reúnen condiciones

ni de seguridad y que dentro de nuestras competencias evidentemente tenemos que garantizar que esas personas acceso a los derechos que tenemos los demás en ese sentido creo que nosotros tenemos que garantizar de la mejor manera posible que esas personas tengan esa asistencia y tengan acceso a esos derechos durante el tiempo que están aquí tenemos que garantizarlo y por tanto tenemos que evitar ponerles

desde el gobierno vasco se está preocupando el gobierno

por supuesto que sí que habrá circunstancias que se nos escapen de las manos por supuesto que también tratemos de corregirlas y tratemos como decía de garantizar esos derechos para esas

creo que nosotros desde nuestro firme compromiso con los derechos humanos y ustedes lo saben porque en diferentes comisiones lo hemos hecho saber conocen perfectamente cuál es nuestro posicionamiento y creo que no es para nada

que es un compromiso firme que no es de ahora que va en el adn de los socialistas

donde estemos nosotros siempre velaremos por el pleno cumplimiento de esos derechos humanos en nosotros esas personas siempre van a tener unos aliados a través

intentaremos mejorar su calidad de vida durante el tiempo

comunidad no tengan duda de eso es más nosotros no solo llevábamos esas cuestiones en nuestro programa electoral sino que incluso hay un bloque específico dentro del acuerdo de entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco que precisamente es uno de los principales ejes de ese acuerdo de gobierno que es un eje dedicado a la convivencia a los derechos humanos que se traduce también en un plan especifico de derechos humanos y convivencia que se trajo a esta cámara y que afortunadamente tiene respaldo de la misma sin embargo nosotros vamos a votar en contra del acuerdo de transacción por qué lo explico no porque estemos en desacuerdo

errores de forma creemos que hay errores de forma por qué porque esta cuestión se está tratando desde un punto de vista de refugiados y no son refugiados son migrantes hay que tener en cuenta otras cuestiones competenciales normativa creo que esta cuestión no se puede abordar a la ligera como decía hay que abordarla desde un punto de vista de absoluta responsabilidad teniendo mucho cuidado con todas las cuestiones referidas a este tema y por tanto entendemos que hay un error de forma que bajo nuestro punto de vista hace que eso no sea posible el puerto evidentemente no es una frontera claro que no es una frontera compararlo con otras fronteras

en debates perversos de ese tipo creo que tenemos que ser tremendamente rigurosos y tenemos que procurar abordar este debate como decía al principio desde la más absoluta responsabilidad como digo respetando absolutamente y coincidiendo absolutamente como grupo parlamentario socialista con el fondo de la cuestión tanto

el grupo parlamentario elkarrekin podemos puede ser adecuado o no

tengo mi opinión particular pero en fin creo que es una cuestión que en este caso no nos compete a nosotros podremos opinar pero no creo que podamos hacer nada

el propio puerto será quién tenga que tomar la decisión

mejorar aquellas cuestiones que entendamos que sean deficientes pero siempre intentando garantizar la seguridad

que creo que tenemos que ser muy cuidadosos y no tratar ciertas cosas tan a la ligera se han realizado gestiones interinstitucionales me consta que se está trabajando desde el gobierno vasco con los ayuntamientos con las diputaciones con los operadores privados que gestionan la cuestión se están buscando

sean las más adecuadas posibles se está valorando la posibilidad de crear

por supuesto que sí en tanto en cuanto haya personas que estén viviendo en las circunstancias que están vivienda esas personas siempre quedará algo más por hacer yo únicamente

como grupo parlamentario socialista siempre estaremos dispuestos a trabajar en esa cuestión

jaun andreok egun on guztioi el tema que hoy nos trae eh bildu a debate en este punto ha sido ya tratado en este parlamento a iniciativa de elkarrekin podemos en forma de solicitud de información preguntas escritas orales y solicitud de comparecencia a la consejera de desarrollo económico e infraestructuras que en principio se sustanciará el próximo lunes día dieciocho también se ha debatido en las juntas generales de bizkaia

y en todos los casos con el mismo resultado que parece que hoy se adoptará por esta cámara el rechazo de la propuesta de eh bildu que únicamente contará con el respaldo de elkarrekin podemos incluso

del puerto de bilbao el pasado ocho de noviembre dando este cumplida respuesta además de otras reuniones mantenidas por representantes de grupos políticos como ha expresado la señora agirre con otros representantes del gobierno

para abordarlo y entendemos que debemos abordarlo con responsabilidad y dejando la demagogia

ya que nos encontramos ante una realidad de especial sensibilidad estamos

diferenciados que tienen gran importancia ambos para nosotros y nosotras

por un lado están las obligaciones legales del puerto y aquí nos encontramos con una situación concreta el reiterado intento de varias personas de acceder a las instalaciones portuarias

ante lo cual por la autoridad portuaria se adopta entre otras medidas la decisión de construir un muro en las cercanías del acceso

del puerto de bilbao por razones de seguridad y este parece ser el motivo de todas estas iniciativas

iniciativa al respecto y al menos desde el dos mil catorce en el que se interceptaron treinta y nueve personas este problema está latente

en concreto la ley de puertos del estado la ley para la protección de infraestructuras críticas y el código internacional de protección de buques e instalaciones portuarias obligan a controlar la entrada y estancia de las personas y vehículos en el puerto que debe estar justificada con la realización de una tarea servicio o transporte relacionado con la actividad portuaria y todo ello independientemente de quién o quiénes intentaran acceder o cuales fueran sus nacionalidades sea

con situaciones referidas a una adecuada atención a situaciones de ayuda o de protección a refugiados o de vulneración de derechos humanos el puerto

donde el tránsito de personas está prohibido y repito independientemente de la nacionalidad que sean

y hay que asegurar la seguridad de las personas que están trabajando en el puerto y la seguridad de las mercancías que transitan por allí existe una exigencia legal al respecto el acceso al recinto portuario debe ser restringido y controlado lo pudimos comprobar la pasada legislatura cuando miembros de la comisión de desarrollo económico visitamos los puertos de pasaia y de bilbao y vimos cuál era el riesgo que teníamos al transitar por esas instalaciones aunque íbamos en un microbús y también la incomodidad

normas internacionales de seguridad ponen en riesgo incluso la seguridad de las propias personas que intentan acceder de forma irregular

señora guanche qué ocurriría en el supuesto de que alguna de esas personas que intentan acceder de cualquier manera

que por cierto ha estado cerca de ocurrir hace escasas semanas se localizaron a tres personas en un contenedor del puerto respirando con unos tubos de plástico a quiénes exigirían ustedes responsabilidad

a tomar esta medida se adoptaron medidas de protección adicionales como la reparación y mejora del cierre perimetral del recinto portuario el refuerzo de los medios humanos y técnicos de la

la contratación de seguridad privada a fin de complementar las funciones de la policía portuaria

vídeo detección el puerto tiene una responsabilidad y una obligación de garantizar la seguridad dentro de sus instalaciones y tiene que tomar medidas al respecto por lo tanto la actuación de la autoridad portuaria obedece única y exclusivamente y necesariamente

en materia de protección de pasajeros y mercancías con independencia de quién o quiénes intenten acceder o cuales fueran sus nacionalidades de estas obligaciones legales del puerto ni

han hablado sobre las mismas sobre su exigencia del cumplimiento dicen ustedes que se vulneran derechos humanos yo les pregunto

qué derechos humanos se vulneran impidiendo el acceso irregular a una instalación crítica como puede ser un puerto o un aeropuerto

se vulneran nosotros sabemos alguien ha hecho esa pregunta sabemos que la construcción de este muro

evidentemente no lo soluciona es un problema más grave pero sí que da pasos en la otra línea que décimos en el otro ámbito en la seguridad del puerto sería ideal que con una raya marcada en el suelo fuera suficiente para delimitar los espacios a los que se puede acceder y no se puede acceder pero bueno no somos ilusos al respecto

la importante cuestión de los derechos humanos de las personas migrantes que se han asentado en el entorno del puerto en este caso se trata de ofrecer condiciones dignas de vida desde una perspectiva de

trágicas y dramáticas o que simplemente migran en busca de una vida mejor eusko jaurlaritzak

interinstitucional formada por el gobierno vasco la diputación foral de bizkaia la autoridad portuaria los ayuntamientos afectados los cuerpos de seguridad la cruz roja y cear que están trabajando para que se garantice la dignidad

los derechos y los deberes de todas las personas trabajando en la coordinación institucional en la asistencia humanitaria informando y asesorando a todas las personas que llegan de las opciones legales que tienen que disponen la prevención considerando el alto riesgo que corren estas personas al moverse

la seguridad en el ámbito de los municipios en los que se están moviendo y la convivencia con los vecinos y vecinas de esos municipios se está trabajando desde la máxima sensibilidad y con la máxima responsabilidad por los derechos de cada una de las personas

o sean ingleses vamos a dejar trabajar a esa mesa interinstitucional no creo que tengan dudas señora agirre y señora guanche de que euskadi es una tierra solidaria

hablamos de cumplimiento de la legalidad y de humanidad hay que llevar acabo ambas no son contrapuestas

de verdad señora guanche el hecho de no levantar ese muro que es el objetivo principal de estas iniciativas considera usted

que es una mejora de derechos y condiciones humanas para estas personas es decir si no se levanta este muro es una mejora para estas personas para las condiciones de vida de estas personas

de los derechos humanos qué es lo que aporta su no construcción a estas personas vamos a garantizar la seguridad y vamos a trabajar con esas personas para que tengan unas condiciones dignas básicas para ello ponen más interés en el muro que en la mejora de las condiciones de estas personas beraz demagogia alde batera

eskerrik asko señor damborenea una anotación nada más el brittany ferries es porque es

se puede migrar por dos razones puede ser por causas personales por amor por trabajo o se puede migrar pues de forma forzada pues por la guerra o por la miseria que vives en tu propio país creemos que emigrar también es un derecho y es lo que hemos venido a defender aquí es un derecho de las personas

he sido consciente no he citado la palabra refugiado he hablado simplemente de personas y nos preocupa mucho el muro evidentemente el muro físico pero después de escucharle casi preocupa más

que tienen porque usted prioriza las mercancías el negocio a las personas y eso es lo preocupante y eso es precisamente lo que nos preocupa de ese muro

en el ferry mientras que hay personas que se están jugando la vida pues por colarse en ese ferry

no sé de resumen de prensa o de documentación pero yo hubiera preferido que me hablase de sus contradicciones de cómo se bueno dígame cómo se casan los derechos de las personas con los

en una posición empática también es la nuestra comprendemos que no es un tema fácil este de afrontar solo insistimos y vuelvo a insistir que el muro no es la solución porque vuelvo a repetir que si una persona es legal a este lado del muro

y ha sido conscientemente yo hablo de personas en mi texto en mi alocución usted no me ha oído eso

la política es en su sentido más genuino ya sea ejercida desde las instituciones o desde la sociedad civil está íntimamente vinculado a los significados de la empatía no solo es la capacidad

la empatía es la experiencia que permite comprender la importancia de perseguir el bien común tanto al menos como el bien particular

pedimos y ofrecemos un compromiso la empatía el ponerse en el lugar de otra persona

usted solo ha escuchado una parte de lo que he dicho y sinceramente que mi discurso le parezca lamentable me halaga porque sé que en este tema estamos en lugares muy distintos de lo cual me siento orgullosa le refresco la vulneración de derechos humanos en ceuta y melilla no será si yo quiero será si ustedes quieren que son quienes tienen en sus manos parar las devoluciones en caliente

de toda la población a las que se le está viendo vulnerado habla usted de personas que asaltan los contenedores que puedan asaltar aviones que asalten el puerto que en inglaterra no los quieren ni ver

hombre por favor cómo se le ocurre a un pobre ostentar de algo fundamental como un teléfono móvil no le da vergüenza de verdad no le da vergüenza

ha puesto las cargas en el centro ha puesto el dinero en el centro no me extraña yo sé de dónde viene y no puedo esperar más pero lo que no le voy a tolerar es que ponga el miedo en el centro porque con el miedo no se ayuda y no se construye esto es una cuestión de derechos humanos

que soy consciente de lo compleja que es abordar una solución para esta situación pero esa solución no puede ser un muro no debe ser un muro

propongo cuando hablo de que el muro no puede ser juntarnos pensar y no apoyar este tipo de acciones me entra la duda de si quitamos de nuestra enmienda la palabra refugiadas y ponemos la ponemos personas migradas o personas sin apellido tal vez apoyarían la iniciativa

en un momento en cualquiera de los casos

con una mano dan una caricia y con la otra una bofetada el señor atutxa que

la capacidad de llevar la voz de este parlamento por el que hay sido elegido al puerto ha apoyado

señor zorrilla le voy a responder a sus preguntas pero antes de eso

ha dicho usted que la respuesta del señor atutxa ha sido sobrada y adecuadamente respondida no sé si le he pillado las palabras exactas en serio lo cree

ha vinculado directamente a las personas migrantes a las personas que hacen eso con el terrorismo de verdad cree usted que eso es responsable qué eso es sobradamente respondido yo

ha dicho usted que algún día va a haber un accidente grave yo también lo he mencionado en mi discurso pero un muro soluciona que esos accidentes graves no vayan a pasar a mi entender puede generar

que pueden ser incluso más graves y de los que todas nosotras

responsables yo le he dicho que soy consciente de la dificultad de armar una solución respetando la legalidad y el cumplimiento

pero el muro no es lo que va a arreglar esto y qué derecho se vulnera se vulnera el derecho humano recogido como número trece en la declaración internacional de los derechos humanos el derecho a transitar a la libre circulación a moverse

de un estado de verdad respóndame usted a la que le he hecho en mi discurso inicial y a la que le vuelvo a repetir ahora de verdad creen que la solución es poner hay que buscar un equilibrio entre el cumplimiento de la ley y el respeto a los proyectos vitales de las personas sin duda pero también a la protección de los derechos humanos esto

tomamos medidas y dejamos a un lado las propuestas que implican represión de la ciudadanía no vamos a encontrar ninguna solución este sábado a las once de la mañana habrá una movilización convocada por el movimiento feminista para decir que la guerra empieza en bilbao

con la carga de armas a yemen empieza en el puerto con un muro que deja fuera a las personas y las aleja de su capacidad de ejercer un derecho humano besterik ez

todo esto viene de este titular un muro de cuatro metros para impedir el tránsito de refugiados del periódico gara

por eso estamos hoy aquí por este titular no estamos por este otro que es del mismo día el ferri se plantea su continuidad en bilbao por la avalancha de polizones

estamos por ese o

tampoco estamos por este ahora bien el derecho a migrar y el muro del puerto de bilbao y que tendrá que ver una cosa con la otra

señora guanche usted tiene derecho a entrar en el puerto de bilbao yo no

yo tampoco entonces de qué derecho me está hablando que se vulnera

sabe usted cuál es el problema real y lo que pidieron la compañía bretona alias francesa

no pidió levantar un muro pidió adaptar la legislación española la francesa

entrar en el puerto de bilbao ilegalmente usted al ser albanes o sea de donde sea o de eibar

eso es lo que pidieron que se cambie la legislación en españa porque es un cachondeo que le detengan a la misma persona diecisiete veces

porque no pasa nada porque es una sanción administrativa y que

ni se tramita como sanción administrativa y ellos lo saben y por eso están aquí y no están en los puertos franceses esto no ocurre en los puertos franceses

que muchos están yendo a vigo para meterse de polizones en barcos que van a canadá para luego en canadá ir a gran bretaña fíjese usted me dice como no van a tener oiga móvil dinero de todo de todo sí hombre hombre sí que sí

con visa con visa de seis meses de turista que sí que sí y usted me dice

desde nuestra perspectiva esta situación tiene connotaciones que resultan difíciles de entender y de exponer claro no es español el que lo escribe y el mismo individuo puede ser arrestado un gran número de veces

que más del noventa y cinco por ciento de estos más de mil sujetos sean ciudadanos albaneses con un mismo perfil varón de quince a treinta años musulmán

a hacer un debate demagógico sobre sí sí sí sobre los refugiados los inmigrantes y este no es el caso y lo saben pero como hubo un periódico que se llama gara que sacó el titular del muro de la vergüenza pues hay que venir aquí

con mucho más motivo oiga esto se acaba si se quita la línea ojo y a lo mejor si no hay muro

porque están perdiendo los clientes por qué porque su carga no llega en condiciones a gran bretaña entonces prefieren embarcar desde otro puerto a lo mejor

no hay problema cuando desaparezca la línea porque la línea no la ponemos nosotros las líneas por si no lo saben o comercialmente son rentables o no lo son

y en el caso que nos ocupa pues después de muchos años hemos conseguido tener una línea porque nosotros queríamos que hubiera una línea

y después de muchos años tenemos una línea solvente y rentable y desde luego en nuestra opinión

lo que hay que hacer es mantener intentar mantener esas líneas y que efectivamente sea competitiva pero sobre todo que sea segura para las personas que viajan
y para la carga que llevan eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

lo que dice yo creo que he sido claro cuando en mi primera intervención he dicho que si me pregunta por mi opinión personal sobre el muro pues tengo la opinión que tengo y a buen entendedor

más pero también es cierto que la ley dice que hay que garantizar una serie de cuestiones y no nos podemos saltar la ley y todos podemos ponernos en una situación muy idílica

pero ahí hay cuestiones de seguridad que creo que hay que garantizar y cuando hablo de seguridad

ni de los pasajeros del ferry sino de esas propias personas migrantes que están ahí y esas cosas hay que garantizarlas y si hacemos un análisis objetivo frio

de cómo se suelen hacer ciertas cosas

en cuenta no vale con decir estamos en contra de que se construya ese muro no hay que analizar todo

con la debida frialdad y con la debida objetividad y creo que ahí no podemos ser irresponsables y caer en el discurso demagógico de ponernos en contra de algo sin valorar otras circunstancias creo que tenemos que andar

nosotros no podíamos pactar nada con ustedes entre otras cosas porque no teníamos

pero en cualquier caso no tengo ninguna duda en que si en otro momento se traen este tipo de cuestiones podemos jugar de dos

o intentando hacer un ejercicio previo para que el enfoque sea más adecuado y si presentamos enmienda llegar a un acuerdo saben de sobra que nosotros cuando presentamos enmienda

en hablar en dialogar en intentar llegar a un acuerdo o incluso les voy a proponer otro ejercicio que creo

mucho más válido cuando tratemos cuestiones de este tipo en la que además creo que podemos llegar a amplios consensos dentro de esta cámara

antes de registrar una iniciativa de forma unilateral tratándose del tema que se trata el intentar llegar a un acuerdo previo intentar acordar entre todos los grupos parlamentarios

que además de ser mucho más correcto puede reforzar ciertas cuestiones creo que es un ejercicio que lo deberíamos de hacer y en cuestiones como estas creo que es un ejercicio

a que lo hagan y que desde luego si están planteando la posibilidad de registrar cuestiones de este tipo no tengo ningún problema en que nos llamen lo analicemos incluso veamos la posibilidad de llegar a amplios acuerdos para que esas iniciativas sean registradas por el máximo de grupos parlamentarios posibles por nuestra parte no hay ningún problema sino todo lo contrario

un defecto de forma importante y eso es lo que ha hecho que nuestro voto sea contrario pero repito y me reitero en lo que he dicho en mi primera

en el fondo de la cuestión estamos perfectamente de acuerdo y si estamos hablando incluso

medidas o planes de manera mucho más integral mucho más completa mucho más amplia no solo para estas circunstancias sino para personas refugiadas migrantes que estén de paso que no estén de paso que se vayan a quedar nosotros siempre siempre siempre

dispuestos a sentarnos a dialogar y hacer el ejercicio que tengamos que hacer para llegar a un acuerdo lo vamos a hacer siempre siempre siempre y si es de manera integral como se hace por ejemplo en los intergrupos

encantadísimos qué quiere que le diga señora guanche usted sabe perfectamente cómo pensamos nosotros cuál es nuestra sensibilidad y cómo trabajamos por tanto creo que ahí no hay ninguna duda independientemente que hoy vayamos a apoyar o no esta cuestión

el compromiso de nuestro grupo con la defensa de los derechos humanos por tanto pues sí el enfoque puede tener un problema

erróneo en cuanto al concepto que creo que usted lo tiene claro

creo que no ha sido lo más adecuado si me pregunta usted por las declaraciones

no las comparto no las comparto pero me quedo con lo que les he dicho antes con esa voluntad de este grupo parlamentario socialista para abordar estas cuestiones de manera integral y como les decía antes si en un momento dado ustedes estiman oportuno que hay que presentar

teniendo en cuenta lo sensible de la cuestión sí me gustaría que quizá pudiéramos hacer el ejercicio previo para intentar llegar a un acuerdo antes de registrarla y que esa proposición no de ley viniera respaldada viniera firmada

si yo había mencionado la palabra refugiados lo achacaba que había hablado de refugiados

la proposición el texto de la proposición de ley que ha presentado donde habla de personas refugiadas en el punto uno

en su texto y es lo que planteaba sí lo menciona también me decía que le había hecho un resumen de prensa

era significar que en este tema debiéramos tener todos en teoría también lo he dicho toda la información para abordar este asunto con responsabilidad cosa que creo no se está haciendo y se ha hecho con mucha de todas formas para mí ha sido más interesante como no lo he hecho yo el resumen de prensa que su paseo virtual por la planta once del puerto de bilbao y la visión de los barcos desde ahí con todos los respetos hablaba también de los derechos de las personas frente a los derechos económicos también lo dice en su texto

es factible respetar los derechos de las personas y también tener un desarrollo económico

décadas intentándolo nuestro partido con otros partidos llevamos trabajando en esta materia muchos años el desarrollo económico nos ha permitido

que es mejorable por supuesto pero ese desarrollo económico es el que permite tener las políticas sociales que tenemos

para todas las personas y esto lo enlazo con la empatía con la que terminaba

de la bancada que viene no le he contestado antes a la señora guanche cuando hablaba de los muros y comparaba el muro del puerto de bilbao en el acceso de la terminal del ferri con los muros de trump en méxico con el de

ha hecho una enumeración de muros que bueno pues aquí es donde decíamos que no hiciese demagogia

no me va a comparar la seguridad de una infraestructura crítica como es el puerto un puerto con un muro construido en determinado lugar para separar dos países

los muros que menciona son para no permitir la entrada para que no entre nadie son muros frontera entre países este muro paradójicamente

lo hemos dicho antes hablamos de cumplimiento de la legalidad y de humanidad hay que llevar acabo ambas y no son contrapuestas no sé si entienden ustedes que el que está a favor de cumplir la ley y que se construya el muro para garantizar la seguridad en una infraestructura crítica

de los derechos humanos no me han contestado antes qué aportaría a estas personas a las condiciones de vida de estas personas la no construcción del muro qué beneficios les aportaría eso no me lo han contestado

que le preocupaba nuestra mentalidad en esta materia pues yo perdone que le diga pero le devuelvo la preocupación está claro que están en contra de la construcción de un muro

pero quieren que se deje que las personas circulen libremente las personas ya no digo las persona migrantes ni los refugiados las personas yo entiendo que si pueden las personas migrantes en igualdad de derechos podrá cualquier persona que las personas circulen libremente por las instalaciones del puerto

irregular y sin las debidas garantías de seguridad poniendo como hemos dicho antes incluso en riesgo sus vidas

habrá un control de acceso restringido y controlado y también se lo ha mencionado creo que el señor damborenea si estas personas

de dejar que se colasen en el aeropuerto y subiesen a los aviones con destino al reino unido en condiciones de inseguridad o adoptar medidas para intentar que esto no ocurriese un poco de

las instituciones tienen la obligación de evitarlo y los que están aquí entre nosotros nuestra obligación como decíamos antes es hacer todo lo posible y en eso está trabajando la comisión interinstitucional para los que están aquí estén en condiciones humanas dignas y el respeto a los derechos humanos de estas personas

presentamos este documento a raíz de una interpelación que hizo nuestro grupo a la consejera de educación en esa interpelación se hablaron de muchos temas pero hubo uno de los que yo le planteé

que la consejera ni mencionó

y por tanto hemos creído adecuado presentar hoy esta moción

la presentación de esta moción ya lo siento va a ser un poco árida porque va a ser de números pero es que son los números los que nos muestran

en euskadi el treinta y ocho por ciento de las ofertas de trabajo exigen el conocimiento del inglés

en niveles parecidos y según adecco cada año el porcentaje crece es decir estamos hablando de una herramienta fundamental en el campo de la educación orientada hacia el mundo laboral además

el tres de noviembre de dos mil quince actuó como sociólogo presentó su opinión como sociólogo en la ponencia de juventud y dijo literalmente los jóvenes de hoy

que los de generaciones anteriores esto es lo que dijo una persona reputada y que además hace de este tipo de estudios

en la educación en personas capacitadas para enseñar en inglés en la escuela pública solo el trece por ciento de los profesores están capacitados para dar clases en inglés

en la escuela concertada aunque tienen más horas y

mejores resultados tampoco tienen muchos más solo el catorce por ciento de los profesores están capacitados para dar las clases en inglés

por una razón y es que para dar estas clases en inglés no se les exige

be uno si se les exigiera el nivel ce uno como se exige para los profesores que deben dar clases en euskera el porcentaje bajaría

es una exposición de porcentajes de números y de realidades de las setecientos cuarenta

que eran para infantil y para primaria tan solo cincuenta y siete salieron para inglés tan solo cuando todos sabemos que

que se aprenda en nuestro caso ese tercer idioma cuanto antes posible y en el resto de españa en el grupo de edad

el sesenta y pico por ciento de los niños y nosotros sacamos una ope para profesores en esas edades

y de setecientos cuarenta tan solo cincuenta y siete tenían requerimiento de inglés

de otra lengua pues sacamos el mapa

o tercera en nuestro caso y el setenta y pico por ciento de los niños eligen inglés luego esta seguido por el francés el alemán

el portugués pero me voy a referir al inglés porque es el que mayoritariamente se elige y por qué se elige

con la que nos da más capacidad para movernos por el mundo ella y el castellano pero claro el castellano tenemos la suerte de que no tienen

de tenerla ya incorporada a nuestro propio ser imagino que los finlandeses por ejemplo pues tienen un problema tendrán que aprender dos lenguas

la lingua franca que es el castellano y que nos une con cientos de millónes de personas en el mundo la tenemos incorporada por eso me refiero sobre todo al inglés

bueno ya no porque ya ha pasado un año del año pasado a cinco años más se van a jubilar

y es el momento crítico para reforzar

para dar las clases en inglés es una preocupación nuestra y lo traeremos aquí una y otra vez la unión europea

declaró declaró que de todas las competencias necesarias para moverse por el mundo para comunicarse y para atender a los retos de un mundo globalizado

en sociedad en cultura en todos los ámbitos el segundo requerimiento más importante marcaron ocho el segundo requerimiento más importante para todos esos jóvenes era el conocimiento de idiomas

y debido a esta concienciación europea

la comisión europea remitió al consejo que la asumió

que para el año dos mil veinte para el año dos mil veinte el setenta y cinco por ciento de los alumnos debieran estar matriculados en dos lenguas

en dos el setenta y cinco por ciento yo la verdad en esto es que ya ni voy a hacer hincapié porque yo creo que la necesidad venía sobre todo para países que tenían lenguas muy minoritarias finlandia noruega chequia verdaderamente necesitan dos linguas francas nosotros como una de ellas ya la tenemos que es el castellano un tesoro que no sé si es suficientemente valorado en esta cámara es un tesoro pues ya solo con que aprendiéramos inglés nos podríamos relacionar en este mundo pues yo creo que con el sesenta por ciento nos quedaría el chino mandarín pero el chino mandarín

en su país decimos que es una lingua franca cuando se habla no solo en el país propio sino en otros entonces

dos lenguas extranjeras no lo tenemos pero bueno como ya tenemos el castellano pero nos puso otro requerimiento

y es que de esas dos lenguas que debiéramos estar aprendiendo una de ellas una de ellas al acabar

el cincuenta por ciento de los estudiantes debiera hablarla con un nivel be uno por lo menos

y de no tener y que el viajar a otros países no le supusiera

entonces íbamos a ver cómo vamos nosotros

el cuarenta y siete por ciento de los alumnos en el resto de españa se ha llegado al veintisiete

excepcionalmente bien pero es que en euskadi no damos los datos no damos los datos y el consejo escolar de euskadi manifestó abro comillas esa meta está muy lejana

señores no están ustedes cansados de que en educación vayamos a la cola de todo a la cola de todo tenemos los últimos resultados de nuestras propias evaluaciones del ivei no remontamos tenemos las evaluaciones que ha hecho

tiene un acrónimo que en estos momentos no recuerdo pero que nos vuelven a poner esto ha salido hace un mes a la cola de todo son peores que los de pisa dos años después

no están ustedes cansados porque nuestro grupo está cansado defraudado y enfadado y enfadado y en una herramienta tan básica como es

y ustedes quizás estén pensando en la globalización económica que no que hay una globalización social hay una globalización cultural

hay incluso una globalización de derechos humanos todos los

que pertenecen a ong y tienen que viajar por el mundo

cuando van a un país en el que trabajan país africano por ejemplo pues probablemente hablaran en inglés o sea que la globalización no

hacía la ciudadanía mundial en todos los aspectos y yo la verdad es que nosotros estamos ya francamente

cansados el informe del dos mil dieciséis del consejo escolar del estado

muy muy atrás respecto del resto en lo que

en las cifras que les daba antes en el resto de españa

el ochenta y uno coma nueve de los niños

están aprendiendo inglés el ochenta y uno coma nueve de los tres a los seis años en euskadi no llegamos a la media

en primaria de los seis a los doce años en el resto de españa el aprendizaje del inglés está

la escuela pública vasca es la número once de las diecisiete autonomías es decir tenemos diez autonomías

por detrás de nosotros solo quedan cinco no

y les enfurecen a ustedes estos datos si añadimos la concertada a la suma subimos ligeramente en vez de tener cinco por detrás tenemos seis subimos solo un escalón pero porque hago yo aquí esta diferencia entre

pues no para poner peor a la escuela pública sino porque si hay una herramienta en la sociedad

que palabras muy burdas y buscando el masculino genérico con permiso de elkarrekin podemos eso garantiza que el hijo

no está condenado a ser pobre eso es la movilidad social y que el hijo de un hombre adinerado

porque va a tener que competir y cuál es la herramienta fundamental para producir esa movilidad social en una sociedad la educación la escuela pública vasca

más dotada no de dinero no estoy hablando de dinero pero mucho más dotada de voluntad para conseguir esa movilidad social estoy ya corriendo se me está acabando el tiempo

algunas cosas más en la siguiente intervención y sobre todo hablaré de la formación profesional donde el tema

de conocimiento de la lengua inglesa es incluso superior a las personas que egresan de una universidad gracias señora presidenta

orokortzeari dagokionez en lo que respecta a política lingüística en educación el posicionamiento de elkarrekin podemos no ha cambiado y seguimos manteniendo la idea de que los modelos lingüísticos están agotados

de un modelo trilingüe en las aulas vascas pero como ya dijimos en marzo nosotros no consideramos que debemos de ser quienes marquemos cuál debe ser esta tercera lengua sino que debemos de dar la opción a los centros de que sean ellos quienes decidan el proyecto lingüístico más acorde con su particular realidad

recoge la mayor parte del alumnado de todas las etapas educativas no universitarias excepto formación profesional y el porcentaje tanto más elevado como más reciente son las opciones de matrícula de las propias familias inversamente el modelo a

hasta el momento se consideraba que en función del modelo en que se estudiaba los resultados en materia lingüística variaban sin embargo los resultados de las últimas evaluaciones han mostrado que

se ha comprobado que el sistema de modelos lingüísticos no funciona de hecho

el informe de la última evaluación diagnóstica y afirmó que ni siquiera el modelo quinientos garantiza la competencia lingüística en euskera lengua que a nuestro parecer

asimismo la consejera matizó y cito literalmente que ello

sino que también tiene que ver con lo que ocurre en la calle y en casa y si bien estamos de acuerdo con que efectivamente la escuela no es el único espacio

sí creemos que responsabilidad de este gobierno tomar las medidas necesarias para asegurar que el uso del euskera entre el alumnado se dé también en el entorno escolar es decir

presentados confirman que pese a que el centro escolar es el lugar que más euskalduniza a los jóvenes tiene límites y no llega a todas partes así aunque el porcentaje de horas en las que utilizan el euskera los estudiantes de cuarto de primaria ha crecido tres puntos en cuatro años del cincuenta y seis coma cuatro al cincuenta y nueve coma cuatro y dos coma cuatro en segundo de la eso

baja hasta el cuarenta coma nueve en primaria y al veintitrés coma seis en secundaria con la adolescencia horregatik gogora ekarri behar da legeari

en los modelos lingüísticos de la enseñanza obligatoria cambios con el objetivo de lograr que la mayoría de alumnos consigan adquirir las competencias básicas y que su dominio del euskera y castellano

internacional y plausibles en las políticas lingüísticas es cierto que existen una serie de variables que son más importantes que otras a la hora

en nuestro sistema entre red pública y concertada o privada subvencionada

los tres modelos lingüísticos a b y quinientos la distribución en las redes al cincuenta por ciento

actual la enseñanza pública obligatoria se decanta hacía el modelo independientemente de la situación lingüística de las comarcas y del índice de euskaldunización de sus progenitores

tanto en resultados de competencia lingüística como en competencias básicas y cuál es la causa fundamentalmente la acumulación de aspectos relacionados con el

por el contrario la enseñanza concertada se distribuye homogéneamente entre los modelos

más acorde con la realidad sociolingüística del país quedando el modelo a diez por ciento asociado a centros de élite que también decrecen asimismo nos parece oportuno rescatar una de las conclusiones del proceso de experimentación del marco de educación trilingüe proceso met desarrollado entre los cursos dos mil once y dos mil catorce en el que entre tanto se contrastó que la decisión de ampliar el número de horas

no afecta de manera significativa a los resultados en euskera y castellano dicho de otro modo los resultados en comprensión lectora en euskera del alumnado de los

no había afectado negativamente en sus resultados en esta competencia

ampliaron la presencia del inglés en el currículo mostraron un nivel competencial en esta lengua

que solo impartieron el inglés obligatorio dicho esto la enmienda a la totalidad que habíamos presentado a la moción presentada por el pp se centraba en el necesario desarrollo de un plan estratégico

y comenzar a caminar hacia el desarrollo de un modelo trilingüe a partir del proyecto educativo lingüístico de cada centro dentro de unos mínimos comunes y con el euskera como eje

a apoyar a los centro educativos y ayudarles a diseñar su propio proyecto lingüístico

y en tercer lugar proponíamos e instábamos al departamento de educación a promover un irale en inglés para el profesorado con el objetivo

de manera progresiva como saben hemos firmado una transacción pero incidir en que no podemos permitir la fosilización de los modelos lingüísticos por lo que desde elkarrekin podemos apostamos por un nuevo marco lingüístico que se adapte a la nueva realidad y responda a las demandas de la sociedad actual nosotras apostamos por un modelo trilingüe

y elaborado a partir de un proyecto educativo lingüístico de cada centro un modelo que garantice que al acabar la enseñanza obligatoria el alumnado sea competente para comunicarse en euskera

tanto de forma oral como escrita podríamos hablar de alcanzar un nivel de be uno para la tercera lengua y un be dos en euskera

además también tenemos claro que el aprendizaje de cualquier idioma debe ser en base

es decir no aprender la lengua sino aprender cosas

que se mostrado eficaz de cara a conseguir los objetivos marcados en definitiva desde elkarrekin podemos creemos

es avanzar hacia escuelas sin segregación ni de carácter social ni lingüística tenemos claro que no queremos políticas educativas ni lingüísticas que excluyan

no a los modelos lingüísticos y sí al derecho a decidir en los centros educativos el proyecto lingüístico de su propio centro mila esker eskerrik asko macazaga

presentada por el pp en teoría por la política educativa del gobierno pero en realidad no se hace un recorrido como tal por la política educativa sino que se centra sobre todo en el inglés algo que quiero agradecer a la señora bengoechea porque sabe usted que los socialistas vascos estamos muy cómodos en este debate de la enseñanza del inglés porque es cierto

pero es verdad también que esta lengua es vital en un mundo internacionalizado como el nuestro

en esta materia no nos podemos permitir el lujo de retroceder o quedarnos inmóviles ante un mundo globalizado en el que cada vez el dominio de la lengua inglesa es más común más extenso y necesario porque los mayores perjudicados serían sin duda alguna nuestros alumnos y por ende nuestra sociedad sobre este tema además los socialistas tenemos mucho recorrido y podemos hablar con convicción de ello

cuando se inició el marco educativo del trilingüísmo y se inició cuando la coyuntura económica no era precisamente la mejor ni la deseable y aún así se apostó

no solo pusimos en marcha el marco educativo del trilingüísmo sino que promovimos ya entonces iniciativas en el periodo vacacional de los alumnos para mejorar su competencia lingüística en inglés se abrieron becas en el extranjero y se impartieron también cursos de verano llevamos a cabo proyectos para mejorar el nivel de los profesores de inglés

pero no fueron solo proyectos dirigidos a los profesores de inglés sino que también participaban profesores que impartían otras materias para aumentar su conocimiento y su competencia

puntera y ejemplar el inglés sin duda alguna usted lo decía también es la lengua que abrirá las puertas del mundo actual

la lengua común para toda europa además de ser la competencia transversal para un puesto de trabajo

y está resultando ser cada vez más importante para desenvolverse en europa y en el mundo también para acceder a la educación superior y a la investigación en educación es cierto que nada puede consagrarse de por vida porque avanza

pero el inglés seguirá siendo una competencia básica y esencial las familias

pero es verdad que las familias quieren seguir estudiando en trilingüe se ha hecho mucho por el inglés hemos ido construyendo y queremos seguir avanzando pero teniendo como eje el euskera nuestro sistema educativo vasco tiene carácter bilingüe porque las dos lenguas cooficiales son nuestras son propias y tenemos que mejorarlas

a pesar de lo que muchos puedan opinar tiene más facilidades para aprender una tercera lengua

de cuál sea esa tercera lengua tenemos que configurar una sociedad bilingüe con un buen conocimiento de nuestras dos lenguas oficiales y un buen dominio del inglés como lengua internacional porque es la lengua de la ciencia de la empresa del mundo laboral la lengua del mercado internacional de este mundo globalizado el sistema vasco tiene la suficiente capacidad y madurez para dar pasos sin correr ningún riesgo

y trilingüe solo hay que avanzar y mejorarla porque es verdad que tiene todavía un amplio margen de mejora y un ejemplo es el avance del euskera

a medida que han ido pasando las generaciones más conocimiento del euskera ha habido

en los jóvenes se debe fundamentalmente a un esfuerzo realizado por todo el sistema educativo vasco en su conjunto de impulsar el conocimiento y el uso de este idioma

de padres y madres y es cierto que hay que seguir mejorando el euskera su conocimiento y su uso

queremos una sociedad bilingüe y que pueda usar con normalidad y como forma de vida ambos idiomas

pero que sepa usar correctamente el inglés y se pueda desenvolver en cualquier situación y parte del mundo y eso todavía por desgracia está lejos de conseguirse

deben usarse como herramientas del proceso de aprendizaje como materia y como medio de transmisión al mismo tiempo todos los alumnos tienen que tener acceso a todas las lenguas independientemente de su nivel socioeconómico igualando de esta forma todas las brechas sociolingüísticas el impulso del inglés debe ser de forma que todo el mundo pueda acceder al inglés en su centro educativo que todo el mundo pueda tener becas internacionales

al margen de su renta porque todo alumno debería tener la posibilidad

competente evaluada y generalizada se necesita una apuesta por el inglés una propuesta que se pueda generalizar a todos los centros educativos independientemente

un marco amplio y flexible en el que sobre la base de unas condiciones y características comunes cada centro escolar pueda construir su propio proyecto educativo trilingüe

garantizando siempre a las familias el derecho a decidir la oferta educativa pero también hay que mejorar la formación del profesorado que al fin y al cabo

hemos presentado una enmienda con el partido nacionalista vasco y finalmente hemos llegado a una transacción con el grupo de elkarrekin podemos que creo que recoge suficientemente

que he hecho previamente se hace una apuesta por el inglés se apuesta por la capacitación del profesorado se habla de la autonomía de los centros y evidentemente se habla también adecuación de los perfiles de trabajo dentro de cada centro

idiomáticas es verdad que lamento que no hayamos podido sumar al partido popular pero en cualquier caso creo que el acuerdo al que hemos llegado en este punto parece que va a recibir un amplísimo respaldo cosa que por desgracia no ocurrió cuando los socialistas planteamos este proyecto

a lo largo de los años eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak

inoiz ez elebitasuna albo batera utzita el objetivo de los proyectos plurilingües debe ser lograr alumnos y alumnas euskaldunes plurilingües es decir

tanto en euskera como en castellano así como un nivel suficiente en inglés u otra lengua extranjera y la consecución de ese objetivo requiere que a la hora de elaborar proyectos lingüísticos plurilingües se parta de la situación sociolingüística de cada lugar que al perfilar los proyectos lingüísticos de cada centro

además consideramos que el euskera debe ser el eje vertebrador de los proyectos puesto que el euskera vive una situación de desequilibrio social que ha de ser compensada el grupo proponente pedía en la iniciativa que al finar la escolarización obligatoria los y las jóvenes tengan una competencia real en inglés

fantástico pero seamos realistas para aprender y tener una competencia real en una lengua la que sea es fundamental practicarla y para practicarla

más allá del ámbito estrictamente académico coincidirán conmigo en que eso no es sencillo en el caso del inglés en nuestro entorno por tanto establezcamos objetivos realistas

nos hablaba de las bondades de otros sistemas educativos de todas las horas que

una lengua familiar una el castellano hablaba de todas las horas que se dedican al inglés aquí y allá y resulta que el informe

y descienden tres puestos en la clasificación con una puntuación de cincuenta y seis sobre cien frente a los cincuenta y nueve puntos que obtuvieron el año pasado resulta que

de veces y con tantas horas de inglés resulta que en vez de avanzar están retrocediendo y nosotros que en teoría

ese mismo informe dice euskadi ocupa el primer lugar del ranking estatal en nivel de inglés por encima de españa y de la media europea basque country sesenta y uno coma noventa y cuatro después viene navarra con sesenta y uno coma veintiocho recuerdo que estas dos

en las dos tienen dos lenguas oficiales y ya más atrás vienen madrid

todo esto que nos ha contado usted euzko alderdi jeltzalearen proposamen politikoan

respeto a este último punto la incorporación de docentes en nuestra enmienda y también

se insta al gobierno a analizar las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que sean necesarias para adaptar progresivamente los requisitos lingüísticos de los puestos de trabajo

de los centros a fin de avanzar en la incorporación como usted decía de docentes capacitados para impartir clases en inglés además de los de la especialidad esta redacción es más ambiciosa más concreta y va más allá de lo que proponía el grupo popular en su iniciativa ya que detalla una medida concreta

más allá de los y las docentes de especialidad la valoración del conocimiento de lenguas extranjeras como mérito es posible así fue por ejemplo en la última ope

para dar un paso más e incorporarlo como requisito es necesario modificar las rpt

atendiendo a las necesidades derivadas de los proyectos lingüísticos de cada centro esa es la manera de garantizar que las personas que se vayan incorporando al sistema como

vamos a ver un número de personas bastante importante que va

en esa incorporación de nuevos docentes al sistema entendemos que es fundamental que ya vengan capacitados y capacitadas para poder impartir inglés pero también otras materias

pide llevar a cabo medidas necesarias para lograr que el mayor número de jóvenes al finalizar la escolarización obligatoria tengan una competencia real en inglés euskal herria bildu aspira y tiene la ambición de implementar medidas para que toda la juventud

no solo el mayor número al finalizar la escolarización tengan competencia real en la dos lenguas oficiales es decir

y en castellano y cómo no en inglés u otra lengua extranjera o en dos lenguas como recomienda europa nuestro objetivo es adaptar

adaptado a la complejidad social actual sin discriminaciones y teniendo en cuenta que nuestra lengua propia el euskera es

también tenemos que tener en cuenta que el modelo actual segrega y afecta y condiciona en el rendimiento el partido popular

se garantice la incorporación de un porcentaje de docentes capacitados para impartir clases

euskal herria bildu trabaja para que las futuras ope sean eficientes y cuantitativamente cualitativas para reducir

lingüísticos de calidad y para ello dotarnos de las y los mejores profesionales que sean capaces de acompañar en el desarrollo integral emocional cognitivo al alumnado y por último le solicita al departamento

para el fomento del aprendizaje del inglés cuando necesitamos renovar el marco educativo y fomentar políticas educativas adaptadas a los nuevos tiempos

de responder a la realidad compleja cohesionar y cumplir la función equilibradora entre la ciudadanía si logramos eso si logramos eso seguro que conseguiremos mejoras en euskera en matemática

escuchado con atención como no podía ser otra forma las intervenciones de los que me han precedido

es que todas las intervenciones

en menor medida pero todas han sido poniéndose en una postura defensiva sobre el euskera

que de sus diez minutos no ha hablado del inglés más que en los tres últimos minutos finales y creo que ha sido ella la que ha dicho que

la introducción del inglés no amenaza los resultados en euskera y en castellano no había traído yo ese dato pero es un dato real

y la introducción del inglés no amenaza los resultados ni en castellano ni en euskera

las personas que han intervenido ha sido para defender al euskera perdón que yo por lo menos no era mi intención tratar de eso

del inglés en fin vamos a ver ahora a las fuentes

para dar los datos que he dado son las del consejo del estado

consejo de educación tanto del estado como de euskadi recuerdo que se me dijo y yo estoy dispuesta a aceptarlo que el país vasco era uno de los sitios donde más inglés se hablaba pero no estamos hablando de eso

porque estamos hablando de educación y a mí lo que no me cabe duda es que una sociedad como la nuestra que tiene un índice socioeconómico y cultural

invierten las familias su propio dinero para que los jóvenes aprendan inglés eso no me cabe la menor duda

todo el mundo a nada que tenga cierta inquietud

en el cole no lo han aprendido lo han aprendido yendo a una academia

y haciendo verdaderos esfuerzos o sea que estoy segura de que aquí se habla

pero no estamos hablando de eso sino de cómo damos en la educación y los datos son los datos el trece por ciento solo de profesores

y siempre si hablamos del nivel be dos no con el ce uno con el ce uno bajamos al ocho por ciento y esos son datos que están

en los informes del consejo escolar de euskadi en el consejo escolar de españa ahora que se habla más inglés vamos yo estoy segura porque mis hijos en el cole no lo han aprendido pero yo les he pagado

luego ustedes han estado hablando todo el rato del grupo proponente plantea perdón el grupo proponente no es el que plantea es la unión europea la que pide no hemos pedido nada que no lo hubiera pedido ya la unión europea

por dos palabras y por un par de conceptos porque ustedes dicen una competencia real tanto en euskera como en castellano así como un nivel

este nivel suficiente para nosotros es insuficiente tendría que ser más del cincuenta por ciento el nivel por lo menos be uno qué otra frase la frase de ir adaptando las rpt a progresivamente a las demandas que hubiera yo creo que este es uno de los casos en que la oferta

a la demanda porque muchos colegios que ahí estamos de acuerdo con lo que usted dice al hacer su planteamiento lingüístico su proyecto lingüístico

si no hay profesores disponibles primero va a tener que haber profesores disponibles para que los colegios se animen a hacer un proyecto lingüístico y luego hay un concepto ustedes aquí hablan de la formación que desde luego es capital pero mire así puedo hablar algo de la fp

de capacitación para dar clases de inglés o clases en inglés en la fp solo se ofertan

teniendo en cuenta que el cuarenta por ciento es uno de los más altos de los profesores en la formación profesional estoy hablando de ikaslan estoy hablando además

de fp por lo menos en la formación publica no reciben ofertas de formarse en inglés porque no tienen la estabilidad

lo reciben el sesenta por ciento que sí tiene estabilidad hay mucho que mejorar pero por estas tres razones no hemos podido unirnos a su enmienda con lo que en otras cosas estamos de acuerdo

pastor jauna zurea da hitza sí brevemente no tenía siquiera
pensado intervenir en este segundo turno pero quizás por lo que yo anunciaba anteriormente cuando allá por el año dos mil diez los socialistas impulsamos

hubo reticencias y muchas resistencias probablemente por un mal entendido sentido de tener que defender el euskera respecto al inglés cosa que es

de los discursos no existe ninguna dicotomía entre el bilingüismo que tenemos en euskadi y el aprendizaje de una tercera lengua en este caso del inglés los datos apuntan lo contrario el hecho de que los alumnos vascos tengan que aprender euskera y castellano

por lo tanto no solo no son incompatibles no solo hay que tener recelo alguno por la

como el inglés que es absolutamente necesario sino que refuerza también la propia enseñanza del castellano y del euskera

sin decirlo claramente sí he visto en algunas intervenciones una cierta reticencia a que la enseñanza

pudiera provocar un retraso en la aplicación de un bilingüismo real especialmente respecto al euskera y no es cierto y creo que debiéramos quitarnos de encima esa resistencia y lo digo

que ha sido un debate constructivo alejado de apriorismos como se ven en otras ocasiones y que me parece es importante que el acuerdo al que hemos llegado que recoge suficientemente

panoplia de opiniones pudiera recibir si no total parcialmente el apoyo también del partido popular como lo va a recibir también parcialmente

que saliéramos de este pleno con el mayor consenso posible respecto a la necesidad de que esta sociedad de que el mundo educativo vasco apueste de verdad

real porque eso no va a perjudicar al euskera todo lo contrario lo va a reforzar y sobre todo va a mejorar de forma sustancial las oportunidades de nuestros niños

nire parte hartzean hori dice la señora bengoechea que venimos con

en absoluto lo único que le he dicho es que es legítimo hablar del inglés estamos dispuestos a hablar del inglés pero lo que le he pedido es que lo haga a partir de nuestro contexto

y es a partir de esa realidad en la que tenemos que empezar a construir el plurilingüismo nuestro plurilingüismo empieza ya por el

y nos hablaba de la necesidad de aprender dos lenguas extranjeras le quiero recordar que la red europea para la promoción de la diversidad lingüística

recomienda que en aquellos lugares en los que existen dos lenguas oficiales más aún si una de ellas es minoritaria y minorizada lo que se está hablando es en vez de uno más dos de dos más uno es lo mismo se ha hablado mucho del be dos del be uno es decir del marco europeo de las lenguas orain baino lehen

el marco europeo de las lenguas es un marco que no está pensado para los sistemas educativos es una referencia pero no puede ser la única para la elaboración de un currículo educativo

es un marco ideado para personas adultas no para niños y niñas y por otro porque ese marco ha sido diseñado para las lenguas extranjeras en este caso

suficiente hitza zela atzerriko hizkuntzaren kasuan ingelesaren kasuan berriro diot para aprender una lengua es fundamental además

y a día de hoy aquí en vitoria gasteiz en euskadi no hay opciones habitualmente para tener un

en inglés por eso nos referíamos a esa cuestión eta egiten denari edo egiten ez denari buruz jaurlaritzak

eta lehen ere esan dut bengoechea andreak dio que no puede ser progresivamente

el gobierno vasco publique una oferta pública de empleo con requisitos lingüísticos por tanto si usted quiere ver una ope en la que se exija inglés

previamente deberemos de modificar las rpt eso es lo que nosotros planteamos en el punto cuatro

de la transacción y como he visto que estaba interesada por la formación profesional y hacía una mención

del compromiso que tiene este gobierno vasco y este departamento con el plurilingüismo quiero recordar que en el mes de octubre podíamos tener información sobre que ciento setenta auxiliares de conversación de lengua extranjera inician esta semana su labor en las aulas vascas el departamento de educación incrementa de ciento quince a ciento sesenta el número de auxiliares de conservación a su cargo para

en la formación profesional si miramos al proyecto de ley de formación profesional que

en esta cámara podemos encontrar un capítulo completo sobre las lenguas oficiales y lenguas extranjeras en la formación profesional y voy a leerle un

y otra lengua extranjera que será prioritariamente inglés teniendo como objetivo alcanzar una capacidad básica y suficiente en comunicación

en cada centro se concretará la estructura de este modelo lingüístico y la distribución horaria de los tres idiomas teniendo en cuenta su proyecto lingüístico su entorno las circunstancias que rodean a cada ámbito profesional objeto del proceso formativo mire usted si tenemos compromiso y somos coherentes eskerrik asko

la pseudociencia de la escolarización por sexos ez da guk esaten dugulako

que segregan por sexos cuando nuestra sociedad no debe de ser una sociedad segregada edo hori da nahi dugun mundua

los socialistas no estamos a favor de la segregación sexual que se produce en los colegios concertados que por suerte son cada vez menos

ni por raza ni por cultura ni por ningún otro motivo cualesquiera que este sea

la presentada conjuntamente con el partido nacionalista vasco instamos al departamento de educación el competente en este tema a que cumpla la norma vigente en materia de conciertos educativos en aras a garantizar la libertad de enseñanza de los diferentes proyectos ofertados en los centros educativos de euskadi me dirán ustedes que es una obviedad que le está diciendo al departamento que cumpla la ley

lo que le corresponde hacer e instamos también a que apueste por una educación que contribuya al desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo el rechazo a toda forma de discriminación y la garantía

que no esté sesgada por el género porque lo importante es la educación que reciban nuestros alumnos

y no podemos sesgar su educación desde niños porque puede repercutir negativamente a su desarrollo educativo o en sus relaciones humanas se pierden el aprendizaje de las relaciones humanas el de la igualdad entre niñas y niños hombres y mujeres la educación debiera de ser en valores inclusiva transversal y contribuir al desarrollo integral de la persona no se piden hospitales para hombres y mujeres

por lo que no debiera haber tampoco segregación en las aulas por género en los colegios concertados además el decreto doscientos treinta y seis barra dos mil quince de veintidós de diciembre en el que se establece el curriculum de la educación básica y su implanta en la comunidad vasca

por la educación rechazando cualquier discriminación los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir la enseñanza básica la educación primaria y la educación secundaria obligatoria en los centros que prestan el servicio público de la educación en la comunidad autónoma del país vasco y este derecho está garantizado por la administración educativa

como titular de los centros públicos y por la iniciativa social

partiendo de la normativa de admisión de los centros educativos tienen que promover la igualdad de oportunidades el acceso al centro educativo ofertando las mismas posibilidades educativas hay que saber trabajar con las diferencias y hacer de ello un beneficio para los alumnos y alumnas

y hay que enseñarles a definir sus identidades normalizar los roles las funciones los tiempos y los espacios pero juntos coincido con usted señora rebeka

y cuanto antes aprendan a vivir en convivencia mejor será para su desarrollo la desigualdad no debe generarse

y menos en la educación porque ahí es donde los alumnos empiezan a relacionarse con otros niños y niñas y aprenden que ninguno de ellos son iguales no hay dos niños iguales ni dos niñas iguales pero sí debieran de tener igualdad total

en los países democráticos los presupuestos públicos no deberían asumir un modelo de educación que dificulte la igualdad como parte de la identidad porque los niños y niñas deben recibir

los mismos valores y el mismo conocimiento dentro y fuera de las aulas por medio de la convivencia y las relaciones en el colegio y eso no se consigue a través de la tabla de multiplicar de un comentario de texto o de la enseñanza de los ríos sería bueno tener en cuenta la iniciativa por ejemplo legislativo popular que se ha registrado en este parlamento este cambio debería hacerse con seguridad jurídica

y es aquí donde los grupos políticos deberemos de ponernos de acuerdo y llegar a acuerdos esperemos con el mayor consenso posible por qué hablo de la seguridad jurídica

los conciertos educativos que se tomen las medidas pertinentes por la administración

con algún colegio concertado que tenía una situación parecida y lo que ocurrió por falta de seguridad jurídica es que han rechazado el recurso de la junta de andalucía y han dado la razón al colegio al que en su día se retiró el concierto educativo por eso lo que se haga

y siendo rigurosos y exigentes eso es lo que hemos querido nosotros reflejar con la enmienda a la que ustedes no han hecho por cierto

asomo de intención de acercarse a nuestra postura y por lo tanto

es con esos criterios mantener la actual propuesta y vuelvo a recalcar

tan complicadas como esta no se pueden tomar alegremente de la noche a la mañana

eta gehitzen du no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a los dispuesto en el artículo dos de la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones

de la unesco gehiago dio en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto

no serán consideradas como constitutivas de discriminación la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimiento de enseñanzas separados

por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres el acceso a bienes y servicios a su suministro

y añade en el considerando diecisiete que el principio de igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios no

las prestaciones o instalaciones compartidas para hombres y mujeres toda vez que

en consecuencia la normativa no considera discriminatorio el modelo de educación diferenciada si se respeta la igualdad de oportunidades del alumnado de ambos sexos

la ley de la escuela pública vasca definió la escuela pública como plural bilingüe democrática al servicio de la sociedad vasca enraizada social y culturalmente en su entorno participativa

al tiempo que señalaba como uno de sus fines asegurar el carácter coeducador de la enseñanza que se impartía y más allá de la escuela pública este criterio de coeducación ha sido perseguido desde hace décadas

no obstante en euskadi siguen existiendo unas pocas instituciones educativas que apuestan por la aplicación de sistemas de educación diferenciada la ley

textualmente para el sistema educativo vasco que las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a conseguir un modelo educativo basado en el desarrollo integral de la persona

el rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por el género además establece algunos objetivos coeducativos que el currículo educativo debería desarrollar y perseguir y en coherencia con este mandato recorrido en la ley

que esta educación debe contribuir al desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos

y la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por el género

en todas sus dimensiones hortaz ez dago inolako zalantzarik

para comenzar mi intervención me gustaría

hacer referencia algo que se nos presenta en este documento aquí se llama todo el rato al tipo de educación que diferencia

una educación segregada mire es cierto que estamos en la época de la posverdad

y lo dice y lo dice y lo dice sin tener ninguna razón sobre todo compartida

es para que nos entendamos todos juntos y este tipo de educación se llama diferenciada no segregada

pero ustedes siguen siguen pero ya saben ustedes es eso la época de posverdad y en realidad la posverdad la inventó goebbels

y con un poco de suerte consigue que sea verdad o sea que vamos a hablar de la educación

mire yo tenía más o menos los mismos datos que ha expuesto la señora

tengo como ella los datos de la unesco los datos de la unión europea los datos

como de la constitución española como de las interpretaciones que ha hecho la justicia sobre la legitimidad o no de la educación diferenciada pero ya que ella los ha expuesto pues no creo que merezca

ahora bien lo que sí quiero decir es que en realidad este debate no es un debate sobre la educación diferenciada

cambiar la ley y probablemente no aquí sino en ese foro donde estamos todos ese foro que a veces pintamos como eso lejano madrid madrid como si todos nosotros no estuviéramos allí también debatiendo y podríamos cambiar la ley pero el debate de hoy

no es sobre la educación diferenciada y les voy a decir porqué miren

hay un principio de democracia que es uno de los más fundamentales pero uno de los menos conocidos que es el siguiente la ciudadanía pude hacer todo

la ley no prohíbe todo pero la administración solo puede hacer aquello que la ley le permite o le mandata este es un principio básico de democracia y es el principio que protege a la ciudadanía contra la tiranía

haga algo debe estar o mandatado o permitido por la ley y muy al contrario los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no está prohibido por la ley entonces yo creo que de eso se trata este debate porque este debate se trata de que ustedes entienden que la administración puede tomar este tipo de decisiones y le han dicho ya que no

en alemania sentencias en españa tanto

como también donde se presentó la ocasión en andalucía la administración no puede decir porque no me da la gana yo ahora o por nobles motivos porque por mis nobles motivos

dejo de subvencionar la educación diferenciada no es totalmente serio es que el proponer esto es

no voy a decir de tiranía porque suena demasiado mayúsculo pero usted está proponiendo y esto es muy serio que la administración haga algo para lo que la ley

específicamente le permite y por tanto no se puede hacer

bale exactamente es lo que le he dicho esto sería un debate sobre la educación diferenciada si usted lo trajera

o lo que fuera pero usted no lo trae como eso usted lo trae diciendo que la administración porque

financiar deje de concertar con los colegios de educación diferenciada pues no se puede hacer

y si quieren hacer un centro de educación diferenciada todo el derecho del mundo porque la ley no lo prohíbe pero la administración

en este parlamento sabrán que esto es así pero la administración solo puede hacer lo que la ley le permite o le mandata hay alguna ley que le permita o le mande retirar el concierto educativo

a un centro de educación diferenciada no lo hay luego no lo puede hacer y eso es lo que le paso a la junta de andalucía que

y luego lo volvió a fallar de esta manera el tribunal supremo

para evitar que se vuelva tiránica sobre los ciudadanos tiene su campo de acción absolutamente acotado por qué cree usted que antes de cada norma hay un párrafo larguísimo

bajo qué leyes bajo qué decretos bajo qué normativas aparece esa normativa por eso porque

no se puede hacer yo creo que poco más queda por explicar y cualquier día sin miedo hacemos el debate sobre la educación diferenciada pero cuando corresponda cuando intenten ustedes traer aquí

pues en el foro que corresponda donde también estamos todos y ahí se discutirá sobre bondades sobre libertades sobre todos los temas pero lo que ustedes piden aquí es imposible porque no hay ninguna ley

o le permita a la administración quitar un concierto educativo porque sí

por estas razones básicamente no presentamos ninguna enmienda a esta proposición y la apoyaremos hace unas semanas preguntamos al departamento de educación para

la financiación de los centros que segregan por sexo en euskadi el resultado fue publicado si no me equivoco la semana pasada

de seis colegios privado concertados que solo aceptan varones o mujeres gaztelueta munabe ayalde arangoya erain y eskibel

al opus dei parece que por aquí también puede haber algún problema el colegio ayalde de bilbao recibe cuatro coma cinco millónes

millónes arangoya cierra la lista pero por si esto fuera poco además de estos trece millónes de euros el departamento de educación ha subvencionado con casi seiscientos mil euros a estos colegios

programas educativos vaya pasta como diría el señor uria para una educación que sí que discrimina y que sí que está haciendo una doble vara

digitales planes de apoyo educativo programas de excelencia y algo que es especialmente sangrante en la situación que tenemos en las haurreskolas también para escuelas infantiles y de mientras qué pasa fuera sopela

probablemente le agrade más al gobierno módulos prefabricados

preciosos destinados que podrían ir destinados a la educación pública no nos pidan por favor y no lo vamos hacer

apoyar con tal cantidad de dinero bueno ni con trece millónes ni con un solo euro estos centros segregadores pero sobre todo estos centros elitistas donde además

a estudiar y ni siquiera tampoco de esa clase media cada vez más mermada en este tiempo que se está debatiendo sobre este

que da pie a esta moción decía que el gobierno seguirá financiando estos colegios porque forma parte del marco establecido y de los consensos

también la señora uriarte creo que se ha mencionado ya mencionaba

discriminatoria no voy a cuestionar porque no voy a enmendar la plana yo ahora al tribunal supremo que esto no sea legal pero que sea de consenso ya permítanme que lo ponga bastante en duda en este debate a través de una información del diario norte encontramos este informe

la verdad que yo tuve ocasión de leerlo hace un par de días y la verdad que me quede

o por lo menos sorprendido primero se alaban las ventajas de la educación diferenciada para hablar de esto creo que voy a obviar el gran trabajo por la igualdad que entes empresas y

siglos y siglos a favor de la igualdad muy cerca de aquí por ejemplo en navarra vamos a obviarlo pues bien en ese informe

a un mejor comportamiento de los estudiantes en general incluso aquellos acaparan más la atención de los docentes dificultando el desarrollo de ellas bueno también destacan como un valor la mayor empatía que se genera con el maestro

con el maestro o con la maestra con la andereño con la profesora independientemente

sobre ello pero lo que ya es de traca es lo que viene ahora

hablan de diferencias físicas para muchos chicos los deportes de contacto físico como el futbol o el rugby etcétera puede no solo ser divertido sino que de hecho ponen la base

amistades más bien las destruye en los colegios mixtos ambos modos de vivir la agresividad chocan cierro comillas

la educación no discriminatoria en serio que este modelo que busca la igualdad se basa en que los chicos nos dedicamos a futbol a rugby no sé si al boxeo también y que a las chicas bueno aquí es verdad que

benetan hau zentzuzkoa dela no habíamos quedado en que había que superar a través de la educación entre otras cosas a través de la coeducacion la actual construcción social

dónde queda además la diversidad de identidades en estos centros no aprobamos todos los grupos la semana pasada una propuesta para hacer una campaña

sobre la compra el consumo responsable de juguetes que no fueran

me pueden decir cómo casa esto con el informe de esta patronal educativa me pueden decir cómo casa esto con financiar a esta patronal educativa con trece millónes de euros me pueden decir

más agresivos que es lo que dicen que no lo digo yo el contacto físico

pilares del cambio de todo esto no es lo que está recogido en la ley no es lo que está en los planes del gobierno por si no queda claro aviso que es retorica que creo que no van a convencer de lo contrario

lo realmente importante es educar en el valor de la igualdad radical entre seres humanos algo lógicamente

defendemos por tanto una escuela coeducadora una formación cívica y ciudadana que impida que la diferencia se convierta

ético formación cívica formación ciudadana de la que debe estar ausente la idea

roles o papeles y que hay funciones o tareas que por naturaleza corresponden a uno de los sexos y no

idea básica de esta ideología segregadora o de esta educación diferenciada no lo digo yo lo dicen ellos tal pasión por lo supuestamente natural

por sexos yo creo que los que se tienen que aclarar son ellos y si no al menos que algunas elites se paguen las consecuencias de su ideología
de su propio dinero no con el de todas eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

según algunos valores debo de ser bastante
bicho raro ya que he jugado a rugby a futbol no sé

por cierto señor martínez en valencia donde creo que gobiernan con su apoyo

más que en euskadi fíjese usted y sabe lo que le pasa pues que van a tener que poner catorce millónes para costear los conciertos con colegios en educación diferenciada esto le ha pasado al consell esto es lo que pasa en euskadi exactamente la misma ley la misma realidad y por tanto aquí el gobierno tiene que concertar si es que así lo piden los centros de educación diferenciada lo mismo que les ocurre a ustedes en valencia exactamente igual eta

es el caso de andalucía en el dos mil catorce la junta de andalucía resolvió las solicitudes para cogerse al régimen de conciertos educativos dejando sin concierto a un centro de educación diferenciada ese centro

y este falló en dos mil quince diciendo debemos anular y anulamos dicha resolución por no ser conforme con el ordenamiento jurídico y declarando el derecho al centro a la vista de esta

ante el tribunal supremo y en sentencia emitida en mayo de dos mil diecisiete el fallo dice se desestima el recurso de casación interpuesto por la junta de andalucía

eso es lo que le están pidiendo al gobierno vasco qué reproduzcamos este guión una vez más

nos piden que repitamos esta experiencia no hay duda del interés del gobierno vasco para que el sistema educativo vasco sea un sistema

sin duda la educación mixta contribuye a promover desde la escuela la igualdad de género pues a través de la convivencia la escuela se enseña desde la más temprana edad a conocer respetar

la diferencia la educación mixta permite fomentar valores y su extensión ha constituido sin duda un avance en el tratamiento de la igualdad de género

es por ello que el gobierno vasco hace una clara apuesta por la coeducación

gracias señora presidenta yo quiero insistir que no voy a hablar

si no es en el contexto de proponer un cambio en las leyes porque vuelvo a repetir que aquí esto lo que estamos hablando es de democracia

al representante de podemos que ha intervenido vamos a ver usted ha hecho

y luego una patronal los nombres de los centros que usted ha citado no pertenecen a esa patronal no sé si se habrá enterado

está pero los nombres que usted ha citado como estando dentro de esa patronal no están

no me parece correcto y adecuado que aquí

nombremos centros concretos por una razón por una razón tan solo y es porque aquí las normas

a un centro concreto aquí las normas se hacen de forma general

lo que está usted intentando es que se tome una decisión

pero es que así no se hacen las cosas las cosas se hacen para todos no contra aquellos a los que les tenemos manía

que por qué usamos dinero público en centros que son

porque hay una cosa que se llama libertad hay una cosa que se llama libertad

de tener de procurar darles a sus hijos la educación que les parece más correcta

y la administración como la ley no le permite se lo he dicho antes ni le mandata quitar los conciertos

yo creo que usted cree incluso luego ha dicho y a colegios que promueven el sexismo y los estereotipos

no se les subvenciona no se les subvenciona y por favor el grupo que apoya al gobierno si ustedes se enteran de que hay algún centro que está siendo concertado que es sexista y que apoya

uno a la señora ubera lo que no me pongo es las gafas de la señora ubera que pretende que usemos todas las mismas señora ubera

o como creador de estereotipos otras personas no lo ven así y sabe al final quién falla la ley la justicia mejor dicho en este caso

denúncielo porque yo me uno a usted si yo también creo que está habiendo sexismo y que se están fomentando estereotipos yo me uno a usted

y yo no pretendo que todo el mundo se ponga mis gafas pero por favor no pretenda usted que todos nos pongamos sus gafas porque la gente es libre libre tal fácil como eso libre

tiene que atenderles a todos y se lo repito la gente es libre para hacer lo que la ley no prohíbe incluso centros diferenciados y la administración no puede hacer más que aquello que la ley le mandata

ni le permite quitar la subvención a los centros concertados

la iniciativa porque nos parecía un paso importante hacia la eliminación de este tipo de educación discriminatoria

en nuestra opinión que es tan legítima como la de todos los demás y sí que antes coincidía con él y muchas veces en educación nos pasa señor pastor que sí

la propuesta y el guante y no sé si el resto de grupos puedan estar de acuerdo que aprovechando el marco de esta ilp que se está recogiendo las firmas y que se ha debatido aquí abordemos esta situación porque

la señora ubera también lo ha dicho es una cuestión de voluntad es una cuestión de que si más o menos estamos todo el mundo

en este tema nos tenemos que poner a trabajar a ello si es lento intentaremos

no tanto pero la cuestión es trabajar en el sentido de eliminar las subvenciones públicas a este tipo de educación segregadora

una moción que evidentemente no es no tiene el carácter vinculante que tiene una ley o un decreto

entonces pues veremos en ese momento si la voluntad que se ha expresado por alguno de los grupos es así y para adaptarlo a la realidad yo confío en los letrados y las letradas

y del gobierno porque sí que hay oportunidades y posibilidades de trabajar en una legislación que ataje esto y también si hace falta trabajaremos en el congreso

sentido la señora berriozabal se refería a la comunidad valenciana mi grupo político que es país valenciano está en el déjame terminar podemos

apoyando con un acuerdo de gobernabilidad en el acuerdo ninguno de nuestros representantes aquí en euskadi estamos de acuerdo con eso pasa algo por decirlo no pues mira se reconoce mira no estamos de acuerdo con lo que están haciendo en valencia ningún problema lo mismo que si un compañero o compañera

partido está haciendo con lo que no estamos de acuerdo eso es lo que hay que hacer cuando

la tribuna del parlamento que conste en acta que no estamos de acuerdo con esa situación

aquí y lo que vamos a hacer aquí hoy es votar a favor de la propuesta de bildu ustedes en contra y

modificar la ley lo que hacen y señora bengochea yo

los nombres por una manía ni por una cuestión de transparencia que pedimos los datos al departamento el departamento los publicó están publicados

ideológico manía yo tengo a otras cosas pero precisamente a la justicia social y a este tipo de educación

de manía persecutoria hacia nadie por tanto repito que votaremos a favor de la proposición de bildu invito

todos podamos estar de acuerdo y repito no

eliminar o quitarle todo el presupuesto a estos centros

nosotros discrepamos de la posición de bildu en relación con este tema para nosotros no es retroceder para nosotros este tipo de iniciativa es un paso a atrás y además

a los debates de esta cámara en relación con el desarrollo del euskera y su implantación y pensamos nosotros que precisamente al revés que la señora ubera que ha sido un paso adelante el hecho de pedir como lo hace la iniciativa una revisión del decreto ochenta y seis barra mil novecientos noventa y siete de normalización del euskera en las administraciones públicas y pensar

adecuación según la reflexión colectiva que supone el marco común de reforma de referencia europeo sobre las lenguas la transacción yo creo que es

la transacción dice que el parlamento vasco insta al departamento de cultura y política lingüística que en el plazo de seis meses analice y envíe al parlamento vasco una propuesta

lo hará el gobierno una propuesta una análisis de actualización del decreto

y que se actualice de quince de abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la comunidad autónoma de euskadi para

la posible incorporación de todos los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas mediante la combinación de sus distintas destrezas además teniendo en cuenta propuestas que forman parte de nuestros consejos y de nuestros institutos en relación

y además se tenga en cuenta entre otras cuestiones la adecuación de los perfiles lingüísticos la optimización del proceso de normalización del uso del euskera y la administración pública eso señora ubera es absolutamente constructivo es absolutamente constructivo ahí no se está prejuzgando nada ya veremos

nos manda la administración definitivamente pero yo creo

que el señor martínez ha hablado es consecuencia el marco común fue una buena noticia surgida de un importante trabajo del consejo de europa

además es que es una cosa internacional no es una cosa

está claro que usted hace y además usted ve con desconfianza la iniciativa y nosotros precisamente la vemos al revés la vemos en el sentido de que es un impulso para precisamente ser más realista ser más constructivo adecuar mejor algunas necesidades en lo que es el euskera en las administraciones públicas

original quedaba pendiente recorrer ese camino y por eso la iniciativa que ha presentado el señor martínez que ha presentado elkarrekin podemos

constructiva y desde luego el acuerdo alcanzado también nosotros cuando presentamos la enmienda de totalidad lo hicimos en la búsqueda de este acuerdo que hemos alcanzado yo lamento que usted se mueva más en el recelo y en la desconfianza y en ver que esto puede ser un retroceso o un freno o un paso a atrás

en el sentido del análisis que podamos hacer cuando el gobierno nos presente el tema la reflexión o nos presente las propuestas o y el análisis en relación

hay muchos elementos que corregir seguramente hay muchas cuestiones que recorrer habrá cuestiones también que haya que impulsar pero todo lo que tiene que ver por lo que nosotros nos hemos informado por lo que hemos visto en relación con la implantación de los modelos o de las claves a uno o a dos es absolutamente positivo en relación con lo que es

es absolutamente positivo y además está absolutamente ponderado en los organismos internacionales que se dedican

al estudio de las lenguas en el ámbito educativo en el ámbito lingüístico en el ámbito

yo creo que hemos firmado una buena iniciativa

y de mejorar ámbitos que igual que ya llevan veinte años y que efectivamente tiene otras referencias en las que apoyarse yo le pido que no desconfíe tanto muchas gracias